define el concepto del sector público vasco incluye los sectores públicos de todas las administraciones públicas vascas la administración general

y las administraciones locales ponemos sobre la mesa una ley integral que creemos que será referencial y que permitirá seguir dando pasos

son de aplicación común a todas las administraciones los contenidos relacionados con la organización son de aplicación exclusiva a la administración general de la comunidad autónoma de euskadi

las instituciones forales y locales tienen competencia y autonomía para determinar su organización promover la cooperación interadministrativa es clave pero siempre desde el respeto a cada ámbito competencial al abordar la organización el proyecto de ley define cuatro objetivos

establecer normas y criterios para el desarrollo de los procesos que configuran la estructura orgánica y funcional de la administración general de la comunidad autónoma segundo definir las entidades que con personificación jurídica pública o privada distinta de la administración general se integran en el sector público de la comunidad autónoma

definir las causas que justifican la participación de la administración general y del resto de entidades integrantes del sector público de la comunidad autónoma en otras entidades

la condición de integrantes de dicho sector público cuarto y último establecer criterios para el estudio y en su caso propuesta de actuaciones en relación con el tratamiento de las posibles ineficiencias

con otros sectores públicos y en particular en relación tanto con el resto del sector público vasco como el sector público estatal aldiz

eraldatzeko eta azkentzeko araubidea ere este proyecto de ley

en un momento en que la sociedad exige limitar la dimensión del sector público la creación de nuevos entes debe someterse a procesos rigurosos y restrictivos

al control público y a la evaluación todo ello está recogido en el artículo cuarenta y cuatro del proyecto para su creación deberá aprobarse una ley de este parlamento o un decreto del gobierno vasco en función del tipo de ente que se trate así no se crearán nuevos entes

queda garantizado eficaz y eficientemente con los entes de que ya disponemos y si se crearan nuevos habría que proceder en caso necesario a reordenar los que ya tenemos

con la creación del registro de entidades del sector público de euskadi en ella deberán inscribirse obligatoriamente las principales incidencias de la vida de los entes

el proyecto de ley prevé un nuevo interesante y útil instrumento la comisión interinstitucional para la racionalización y dimensionamiento del sector público vasco su composición y funciones se definen en el artículo siete analizar la existencia de ineficiencias solapamientos y duplicidades entre los sectores públicos

y en su caso realizar propuestas de actuación para su resolución elaborar estudios y propuestas sobre asistencia colaboración y coordinación administrativa

de las administraciones públicas y de los sectores públicos que la integran en este sentido las cuestiones relacionadas con la evaluación son fundamentales en el proyecto de ley

no se trata ni de una ley de empleo público ni de una ley de transparencia

este es un proyecto de ley del sector público que pretende promover y consolidar el modelo vasco de administraciones públicas

o traumáticas sino garantizar el avance en un proceso de transformación ya iniciado un proceso además alineado con los paradigmas más modernos de la gobernanza europea

señorías buenos días a todos en primer lugar quiero agradecer a la señora garamendi su explicación acerca de la proposición de ley que nos ocupa solamente quiero hacerle una precisión se le ha olvidado decir que esta proposición de ley del sector público es una iniciativa de vox fue toda una sorpresa cuando la junta de portavoces me comunicó que esta era la iniciativa de mi partido

que era nuestra iniciativa se le ha olvidado señora garamendi si no hubiera sido mi iniciativa sino la del gobierno podría estar en facultad de decir que desde vox solicitamos la devolución del proyecto porque no estamos de acuerdo con él no nos gusta pero dado que ustedes me han dicho que este proyecto de ley es de vox les comunico que queremos que directamente sea devuelto

en dilucidar si estamos debatiendo una enmienda a una proposición o un proyecto de ley de mi grupo de vox o es un debate que proviene del gobierno eso es lo que nos hace falta saber además voy a ser breve porque tampoco tengo muy claro los tiempos de intervención hasta ayer a primera hora disponía solo de diez minutos así aparece además en el boletín número cincuenta y siete de la sesión plenaria no me lo estoy inventando sin embargo

la enmienda a la totalidad presentada por nuestro grupo es por todos conocida de hecho se ha trasladado a todos los grupos parlamentarios por lo que no voy a ahondar tampoco en muchos detalles

es que a pesar de este cordón antidemocrático este proyecto no nos gusta eso se lo décimos muy claro igual que les debía ocurrir a muchos otros grupos porque esta ley lleva en danza y sin acuerdo desde dos mil diecisiete

sociedades públicas y chiringuitos que además en muchas ocasiones hacen lo mismo de diferente manera eso sí sirven para tener contento a un buen número de

claro que esta iniciativa es una iniciativa del gobierno enmendada por vox porque si como algunos pretenden fuera de mi grupo

muchas gracias señora presidenta nos ocupa hoy aquí en este punto del orden del día la discusión sobre relativo a

por parte del gobierno de este proyecto de ley del sector público vasco se trata de la tercera vez en tres legislaturas distintas que esta propuesta

al ser un texto digamos antiguo que se concibió hace ya bastantes años pues es un texto que responde a una lógica temporal evidente y sobre todo que está adaptado a la legislación en materia administrativa sobre todo en materia en el aspecto básico a la antigua ley treinta barra noventa y dos como está el equipo de la consejera

el texto que elaboró en su día el gobierno es un texto muy conservador es un texto que lo que hace es transcribir una serie de prácticas que se venían realizando en la administración pública vasca

pero sobre todo es continuista de muchas inercias y de una configuración de la administración pública ciertamente muy tradicional esto a pesar de todas las declaraciones pues que suele hacer el gobierno en el sentido de que es una ley que va a modernizar la administración etcétera pero lo cierto es que analizando el texto pues esa

en absoluto a la vista no se incorpora ninguna innovación relevante como podría ser un estatuto de los directivos del sector público vasco por ejemplo una agencia de reclutamiento y de selección de personal directivo

un régimen jurídico básico de lo que serían agencias ejecutivas o un auténtico sistema de evaluación de políticas públicas y no un sistema de autoevaluación que es lo que incluye

mejor dicho fue sometido en su día a muchos dictámenes algunos del año dos mil quince

de gran interés por la incidencia en la economía que puede tener el sector público vasco

lo cierto es que esta ley no aporta nada nuevo le falta ambición tiene carencias y el texto resulta anticuado por eso no le falta

transmitir al gobierno la necesidad de realizar una reforma importante

hemos decidido ya que es la tercera vez que el gobierno presenta el mismo texto se ve que es que no tiene intención de cambiar nada con lo cual hemos optado por reconstruirle prácticamente la norma hemos optado por esto

setenta ha presentado otro más o menos unas cuarenta y tantas otro grupo

que esto es bastante relevante y sobre todo yo creo que esto debería hacer reflexionar al gobierno sobre el tipo de texto que nos ha traído las enmiendas que hemos presentado nosotros lo cierto es que suponen en la práctica una enmienda a la totalidad que discutiremos en la comisión hay tres tipos de enmiendas le adelanto aquí a la consejera y a su equipo

calidad técnico jurídica del texto que contribuyan a mejorar sobre todo la seguridad jurídica que se dice que es uno de los objetivos de la ley

etcétera y finalmente hay un conjunto de medidas que sí que pretenden efectivamente modernizar la administración pública vasca insisto es muy importante que contemos

sería muy importante que contásemos con una agencia de reclutamiento y selección de personal directivo del sector público vasco que fuera independiente

ciertas tareas que en su momento pudieran ser disueltas automáticamente

los servicios públicos y sobre todo el sistema de reclutamiento tiene

pues pase por lo menos por una comparecencia previa en la comisión correspondiente como se hace en las administraciones modernas por tanto y con esto acabo señorías

autorreferencial y sobre todo yo creo señorías que tenemos que ser ambiciosos e intentar aprobar de verdad en este parlamento aprobar de verdad en este parlamento
una norma que modernice las administraciones públicas de euskadi muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna

sí gracias presidenta bien señorías buenos días egun on guztioi

socialista insistimos en la necesidad y la importancia de esta ley una ley del sector público

que viene a ordenar todos los organismos y los entes instrumentales de todas las administraciones y ello con mecanismos de evaluación y de racionalización en orden a evitar

para organizar toda esa normativa que estructura el sector público vasco al objeto de reducir disfunciones y contradicciones que genera efectivamente

la ley tiene como objetivos principales la simplificación y la eficacia y viene a regular de una forma ordenada y cohesionada todas las administraciones y sus

niveles de nuestro entramado institucional son los instrumentos de ejecución de las políticas públicas de los servicios públicos la ley regula su funcionamiento sus obligaciones

se aporta o se intenta aportar desde luego coherencia cohesión y colaboración en la organización y funcionamiento de nuestro entramado público como digo y también muy importante regula los procedimientos de control y registro de cada una de ellas esta norma afecta a los tres niveles como digo

la modernización de las administraciones públicas y de todas las instancias que interactúan con ellas estoy hablando por ejemplo de centros educativos y de salud concertados o entes privados que perciben más de un cuarenta por ciento de su financiación desde el erario público se trata de organizar mejor y también se trata de seguir

a través de sus impuestos hasta que ese euro vuelve al propio ciudadano bien

o cualquier otro tipo de prestaciones asimismo se señalan fórmulas de atención a la ciudadanía y a la participación de esta porque si hay algo que la pandemia señorías ha puesto

que el discurso sobre la buena gobernanza hacía tiempo que venía manifestando hablo de cooperación hablo de implicación en redes de acción colectiva en espacios de toma

entre otras y se trata en definitiva de mantener la confianza en la cosa pública a partir de una nueva cultura administrativa que es la que reclaman

se garantiza en todo caso la plena libertad de las personas para utilizar cualquiera de los idiomas oficiales que deseen en su relación con la administración y avanza normalización del uso del euskera como lengua de trabajo en el sector público que pasaría por tener en cuenta las especificidades de cada puesto también se pretende un

es necesario señalar también las necesidades a las que nos ha enfrentado la covid diecinueve que ha supuesto efectivamente un importante efecto acelerador en la digitalización tanto en el sector público en el privado pero en el que como todos sabemos

y para ello la ley pretende impulsar garantizar y compatibilizar el uso de los medios electrónicos para canalizar la participación de la ciudadanía y de las empresas en la actividad administrativa

la interoperabilidad y finalmente voy terminando se pone el acento de manera importante en los procedimientos de evaluación de la gestión en definitiva señorías eficiencia

todo ello a los principios de gobernanza actuales por tanto insistimos desde el grupo socialista seguimos manteniendo la necesidad de una ley como esta

con una ventaja de salida y es que incorpora muchas propuestas de todos los grupos parlamentarios derivadas de aquellas de las vicisitudes devenidas en aquel proyecto

así que ahora lo que toca es abordar con serenidad y con

aportaciones incorporadas un debate de enmiendas que espero que sea enriquecedor

también tengamos a la mayor brevedad una nueva ley necesaria que ordene todo el sector público vasco estoy segura que podremos llegar a muchísimos acuerdos gracias

como estructura se refiere a las unidades estructurales en que se organiza la universidad

inicialmente con los centros docentes de la facultad de ciencias de la salud y la facultad de nuevas tecnologías interactivas que se encargarán de la gestión administrativa y la organización de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales de grado

que indica el artículo tres establece las normas generales

que deberá ser concedida mediante decreto del gobierno vasco una vez efectuadas las comprobaciones correspondientes singularmente en las materias

igualmente se contempla la posibilidad de autorizar en el decreto a propuesta de la universidad la implantación progresiva de los cursos de los correspondientes

regula los requisitos de acceso a la universidad para lo que se remite a la normativa vigente en esa materia unibertsitatearen eta zentroen funtzionamendu aldiaz

intitulado memoria de las actividades prevé la obligación de la universidad de elaborar anualmente una memoria de las actividades docentes e investigadoras que se realicen en ella que se pondrá a disposición del parlamento vasco del departamento del gobierno vasco competente en materia de universidades y del consejo vasco de universidades

de acuerdo con la norma reguladora de dicha agencia de calidad

las disposiciones finales prevén la primera la autorización a la persona titular del departamento competente en materia de universidades para dictar las disposiciones precisas para aplicar lo previsto en la ley proyectada y la segunda

el día siguiente al de su publicación en el boletín oficial del país vasco lege aurreproiektuaren bultzada eta tramitazioari dagokionez

adicionalmente en el caso que nos ocupa nos encontramos ante una ley singular de reconocimiento de una universidad privada sometida a una normativa específica vigente durante el período de tramitación que establece los requisitos formales para llevar a cabo tal reconocimiento ildo honetan

kentzea asimismo la ley tres barra dos mil cuatro de veinticinco de febrero del sistema universitario vasco establece en su título

podrá promover el reconocimiento de universidades no públicas

básica de universidades además en el artículo ciento nueve de dicha ley se dispone que el reconocimiento de las universidades privadas se efectuará mediante ley

de dicha ley el gobierno vasco ha impulsado a través de su política universitaria la articulación y cohesión del sistema universitario vasco mediante la definición de objetivos de desarrollo dirigidos al conjunto de las universidades que lo integran

aztertu eta hala badagokio onartu baino lehen como les acabo de indicar en euskera me gustaría concluir mi intervención

se ha realizado conforme a las competencias y las funciones de impulso normativo atribuidas a nuestro gobierno y bajo la realidad normativa vigente

correspondiendo a esta cámara las mejoras que considere oportunas incorporar y previas a su consideración y aprobación en su caso eskerrik asko

eta gure gernikako estatutuari eta unibertsitate sistemaren legeari erreparatuz es un proyecto de ley como décimos en la enmienda que no se puede modificar ni el espíritu ni la letra del mismo porque es un proyecto presentado legítimamente como se ha explicado por un particular por una entidad promotora

de forma crítica si cumple o no cumple con la legislación

y los objetivos también que se fijan en el sistema vasco universitario hau da gure talde parlamentarioaren nahia gaurko osoko zuzenketarekin con rigor con seriedad sin apriorismos como se ha llegado a decir en esta tribuna ocasiones tenemos que decir que también en la tramitación este parlamento no ha tenido toda la información relativa a este proyecto de ley hasta el mes de julio nosotros y otros grupos parlamentarios habíamos pedido el conjunto de la información que el departamento de educación del gobierno vasco tenía sobre este proyecto de universidad y no ha sido hasta julio del dos mil veintiuno fuera del periodo ordinario de enmiendas cuando hemos recibido toda la información

de la ley está en el expediente de los parlamentarios que hemos pedido esa información

no hemos recibido el conjunto de la información digo si no hubiéramos pedido la ampliación de plazo de las enmiendas este parlamento podría haber aprobado

los informes que hemos destacado y de los más importantes para ver si una universidad

vasco un informe que se hace en base a análisis y a criterios objetivos un informe que se hizo el cuatro de abril de dos mil diecinueve utilizando en ese caso sí

pues bien ese real decreto que tiene un nivel de exigencia menor al que está en vigor en este momento de tramitación de la ley ese informe utilizando ese real decreto ley era desfavorable analizó seis dimensiones de este proyecto de universidad y en cuatro de ellas dijo que no cumplía

la que hacía este informe no cumplía ni en la oferta académica mínima

ni el personal docente investigador ni las instalaciones y los medios y recursos sí que cumplía otras dos dimensiones pero la conclusión de ese informe es

podríamos decir por hacer honor a la verdad podría no decir esto que me voy a decir en este momento en julio recibimos esa información

que se detectaban en ese informe han podido ser resueltas podrían nosotros no tenemos esa capacidad para certificarlo lo tendría que hacer de nuevo

respecto a la opinión de las universidades del sistema vasco universitario

upv ehu deusto y mondragon solo deusto no se opone a la tramitación y no alega ni presenta ningún informe contrario al reconocimiento de este proyecto como una universidad

komentatzen ditu bere txostenean desmonta con datos de lanbide no con datos propios sino con datos de lanbide la supuesta demanda de los grados que ofertaría

y estamos de acuerdo con esa propuesta y creo que todos los grupos parlamentarios deberíamos estarlo que si esa demanda realmente existiera la upv

asumirla con total tranquilidad con garantías de calidad y de excelencia como todo lo que hace

que es y para eso está también las normas que hace el gobierno vasco y podríamos en ese sentido fortalecer

a la hora de debatir sobre este proyecto de universidad es la entrada del ánimo de lucro en la enseñanza superior reconocida en euskadi es un debate que nos parece central dice la universidad de mondragon en sus alegaciones el gran cambio que supone

y el funcionamiento del sistema universitario vasco que además se hace desde una iniciativa totalmente ajena

superior que afecta a la estructura y al modelo universitario que se ha desarrollado en euskadi que está recogido en la ley del sistema vasco universitario y que se ha

años un modelo sigo citando en este caso que se erige en muchas ocasiones como modelo de referencia en todo el estado español por la consistencia y la orientación y la planificación

estuvimos en la ponencia de ley tuvimos varias comparecencias orokorrean esan dezakegu eta laburbilduz agerraldi gehienetan hau

vera sacristán coordinadora del observatorio de universidades afirmó para definir el proyecto de euneiz que euneiz es un proyecto

es un calco de unos centros adscritos a unas universidades catalanas que son las mismas titulaciones

no ofrecen por ejemplo programas de docencia ni de investigación y que esto es un gran hándicap para el desarrollo y la creación

pedagogía y didáctica de la universidad de a coruña afirmó lo siguiente

de universidad es completamente excesivo para un proyecto que es muy reduccionista en cuanto a ámbitos y áreas de conocimiento que se van a impartir y sobre las que se va a investigar o supuestamente se va a investigar y a centrar

creo que estamos ante un centro de formación profesional superior un instituto superior o él llegaba a decir que en el mundo anglosajón esto se conocía como un college enrique díaz profesor de la universidad

que es la mercantilización de la enseñanza superior y en este caso el reconocimiento oficial por parte del gobierno vasco y si se aprueba esta ley por parte del parlamento vasco

vasco y alertaba sobre la burbuja que se estaba creando en ese sentido en el conjunto del estado español que no somos ajenos en euskadi pero hemos estado blindados porque no se ha reconocido ningún proyecto de estas características cosa que por ejemplo ha pasado como vulgarmente se dice como champiñones en la comunidad de madrid en los últimos años

munduan junto a ello y uno de los temas fundamentales junto al ánimo de lucro pero que es intrínsecamente relacionado es

estamos hablando de que se va a reconocer ahora mismo una universidad privada con ánimo de lucro que según los propios promotores en esta casa en este parlamento

al año en esos cursos por tanto la pregunta es

en la ciudad de gasteiz en el país vasco para qué vamos a reconocer esta universidad que va a pagar

estas matrículas tan escandalosas en este momento pudiendo tener esta misma oferta en el sistema público a precios accesibles y equitativos para todo

autorización de universidades y centros universitarios y acreditación institucional de centros universitarios

legislación vigente en este momento de tramitación de esta ley se acaba de decir este proyecto de ley se tiene que tramitar en base a legislación vigente en el momento de tramitación del proyecto de ley estamos en el momento de tramitación del proyecto de ley por tanto este real decreto está en vigor para este proyecto de ley

se ha entrado en vigor en el mes de agosto el real decreto

en los principios iniciales en la exposición de motivos una definición que voy a leer aunque sea larga porque me parece fundamental para entender lo que es la

no solo dejar hacer dice que la formación de futuros profesionales la investigación la transferencia de conocimiento la formación de ciudadanas y de ciudadanos

y la generación de pensamiento crítico estas funciones son las que confieren sentido último a una universidad como una institución multidimensional

esta visión holística que esto también salió en las comparecencias de la universidad actual comporta que los requisitos de calidad del sistema universitario garanticen unos niveles adecuados especialmente en docencia e investigación funciones esenciales a partir de las cuales convergen el resto de las que cometen las instituciones universitarias

establecidos para el reconocimiento de las universidades privadas reconocimiento que además tiene carácter constitutivo

y voy a decirlo no se ajusta al menos en uno de los requisitos y en el fundamental para reconocerse y considerarse una universidad ya que no cumple con la oferta mínima de titulaciones

seis títulos oficiales de master y dos programas oficiales de doctorado cosa que no pasa en el proyecto no se ajusta a este real decreto ya que tiene una oferta académica más reducida y vuelvo a decir decía exactamente lo mismo con la legislación anterior que era un real decreto exigente y hemos mencionado además queriendo solo uno de los incumplimientos el que nos parece más evidente el que no tiene ningún tipo de apelación pero el resto sin embargo pensamos que deberían de ser acreditados por los organismos que tengan asignada esta función en este caso

del estado se ha dicho en la tramitación se ha dicho hoy también que este decreto establece un periodo de adaptación de cinco años en su disposición transitoria primera para las universidades y centros universitarios que estén autorizados o que estén creados o que estén reconocidos pero no autorizados no es el caso estamos ante un proyecto de ley que está en tramitación ha pasado

nunca ha hecho ninguna apelación ha cumplido la legislación lo que tenía que hacer pero esta

autorizada es un proyecto de universidad y que pensamos que en este momento lo que tiene que hacer si quiere seguir adelante es adaptarse a este real decreto y presentar otra memoria y el gobierno realizar otro proyecto de ley y además lo hacemos no es el primer día que lo décimos eso no se nos puede achacar no es cabezonería ni siquiera es una defensa de la enseñanza superior a generar ánimo de lucro que

meses que se sabía que el gobierno vasco lo sabía

que los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno lo sabían que el resto de grupos parlamentarios también

durante este año y que podía aterrizar en mitad de la tramitación de este proyecto de ley sabían que iba a pasar por el consejo de ministras y el consejo de ministros y ni la empresa ni el gobierno ni el resto de grupos parlamentarios

sobre esto y nos parece fundamental porque puede haber posteriormente pues lamento sobre no haber seguido la legislación vigente en este momento

a los promotores de la iniciativa decir que este proyecto no iba a recibir dinero

de la empresa dijo que este proyecto solo se iba a realizar con recursos privados que no se iban a pedir subvenciones públicas

nada nuevo el dieciocho de mayo no está aquí el señor azpiazu pero sí que está el señor consejero de educación el gobierno

la actualización del programa euskadi next y ahí se incluyó un proyecto

capital son si no me equivoco más de sesenta millónes de euros la mitad de esos son privados y la otra mitad serían públicos además a ese proyecto

comprometido por parte de la diputación de araba y el ayuntamiento de gasteiz sé que

del gobierno como por parte de la entidad promotora desligar este proyecto de araba sport capital del proyecto euneiz pero permítanme algo es un proyecto que tiene la inmensa mayoría de los promotores son los mismos que se va a desarrollar en las mismas calles y plazas de araba

avanzada en investigación y emprendimiento en materias relacionadas con el deporte de élite primera casualidad con la oferta académica de la euneiz con la salud

y con las nuevas tecnologías tercera casualidad con la oferta educativa que dice

baskonia tres casualidades podemos creer podemos cerrar los ojos y no ver la realidad que tenemos

este proyecto si se concede y si no estoy seguro de que se va a sacar

recibir treinta millónes de dinero público para financiar carreras a ocho mil euros para financiar un college international

para pagar el deporte de élite con dinero público por eso pensamos que esos más de treinta millónes de euros como hemos dicho en la enmienda de totalidad podrían ir

al campus de deporte de araba y a desarrollar por supuesto una universidad pública en el que puedan acceder todos los vascos y todas las vascas todos los gasteiztarras y todas las gasteiztarras y no solo aquellos que se puedan pagar

de ley al gobierno lo pedimos al conjunto de la cámara y lo pedimos especialmente a los grupos parlamentarios que se

buenos días me ha parecido procedente salir en el turno en contra de la enmienda de totalidad por la discrepancia absoluta en la valoración en la redacción en la concepción que el grupo proponente de la enmienda ha realizado en esta

de totalidad que todos hemos estudiado y todos hemos analizado efectivamente esa visión catastrofista de lo que es la iniciativa privada las posibilidades en el ámbito educativo de colaborar de compartir de crear de ampliar los ámbitos educativos o universitarios desde luego

en contra y sí que compartimos en este caso la iniciativa del gobierno compartimos la iniciativa del gobierno trayendo este proyecto de ley y sobre todo compartimos la iniciativa del grupo eusteiz

como promotora de esta nueva lo que queremos y que pensamos que va a ser nueva realidad

de euskadi estamos ante lo que supone una buena noticia para vitoria para el país vasco eso está bien claro este proyecto

el hecho en sí de que se creen nuevos ámbitos y espacios que trabajen en favor de la educación

la investigación siempre son beneficiosos para la sociedad en la que se enmarcan el objeto de esta universidad es ese trabajar por la educación por la investigación

que está en lo que la experiencia además de esta universidad acarrea en este caso estamos hablando de una nueva universidad con nuevas titulaciones

y con capacidad de atracción de estudiantes de todas partes que también es importante y estamos hablando también de una importante y eso es muy significativo una importante y exclusivamente inversión privada para que se materialice este proyecto educativo universitario

en cataluña y ahí está la experiencia también que fundamenta el hecho de que podamos traer aquí y beneficiarnos de esta nueva experiencia universitaria

se convertirá en una nueva oferta educacional en sectores nuevos en sectores además estratégicos que hoy no están en el país vasco la universidad podía haberlas añadido a sus titulaciones pero no lo ha hecho

y esta sí que nos la propone o sea que sectores nuevos y estratégicos que hoy no están en el país vasco posicionará a vitoria además en el mapa

internacional lo cual es de agradecer también en relación con una iniciativa además en ese mapa universitario gracias a acuerdos con otras universidades que ya tiene el grupo promotor y que están funcionando vuelvo a decir con éxito y con excelencia universitaria

estudiantes de otros países y además creará una cantidad importante de empleo de calidad lo cual también tenemos que agradecerlo en estos momentos mi grupo el grupo popular ciudadanos lamenta profundamente la desconfianza que algunos otros grupos parlamentarios entre ellos el redactor de la enmienda de totalidad

con la iniciativa privada en el ámbito de la educación es una actitud restrictiva laminadora de la iniciativa privada

que nosotros no compartimos la expresión privada también ligada a la educación ha enriquecido nuestra capacidad de enseñanza a todos los niveles en el país vasco a todos los niveles qué vamos a decir de los

de los que estamos hablando pero de la calidad de los centros concertados de los colegios concertados que nosotros tenemos las ikastolas privadas los ejemplares centros de formación profesional que tenemos

que conciertan con la administración de iniciativa privada o sea en ese caso y ahí están

no tienen no son públicas la universidad de deusto la

que ha sido muy buena para euskadi y para nosotros en el ámbito de lo educativo en el ámbito de la universidad o sea que

esencialmente en la educación y además en todos los niveles educativos la colaboración con la administración educativa

el consejero supongo que mucho mejor

muy bien en beneficio de miles y miles de estudiantes de euskadi y de fuera de euskadi también esa desconfianza en lo privado

en todas sus partes y en todos sus apartados y nosotros no lo compartimos en absoluto no pensamos en absoluto como dice la enmienda que haya falta de transparencia

de tramitación de esta iniciativa no es como otras iniciativas que nos somete el gobierno o los grupos a lectura única y a trámites urgentes esta ha tenido mucho tiempo o sea que si alguien detectaba algún defecto

y se le habrá entregado o sea que en ese sentido falta de transparencia no se puede decir cuando esas cuestiones se subsanen falta de transparencia sería que usted no recibiera la información que usted ha pedido pero

esa parte de la enmienda de totalidad se descalifica por otro lado como todo proyecto este también ha tenido su andadura su andadura todos los proyectos de ley vemos que tienen su andadura desde que son borradores desde que son

sus informes se van haciendo se van identificando las insuficiencias o los defectos o que es contrario a la normativa

su andadura ha tenido que superar insuficiencias usted las ha puesto de manifiesto y también las hemos conocido porque ha habido comparecencias en ese sentido pero

para definitivamente conseguir el visto bueno conseguir el pronunciamiento favorable

agencia de calidad del sistema educativo vasco a su representante

al impulso de este proyecto de ley al impulso de esta nueva universidad y en ese sentido pues ahí están las cuestiones y además después de todo eso

noticias normativas que se han tenido en relación con este tema pues así lo ha valorado también

presentación del proyecto que ha hecho el señor consejero ha seguido adelante con su tramitación

no lo ha retirado lo cual avala que el proyecto pues cumple con lo que pues bueno pues la cojua y con lo que las oficinas jurídicas del gobierno pues entienden

o sea que hay oportunidad necesidad nosotros entendemos que también pero oportunidad por lo menos en el proyecto de ley además las enmiendas presentadas por los grupos que apoyan al gobierno pues certifican que son

pero nada más son unos cambios técnicos efectivamente de adecuarse a algunas necesidades normativas

en lo que van a ser exigencias de esta nueva universidad exigencias

en este proyecto de ley por otro lado se está hablando como concepto descalificador y mal utilizado del ánimo de lucro algo que señor martínez no es así ya que lo que procede además en este momento y lo que tiene que dar satisfacción y credibilidad al proyecto

lo que van a hacer que es realizar una serie de inversiones millónarias en vitoria en relación con la puesta en marcha de este

millónarias para generar estructuras para generar organización para generar empleo para

un proyecto de universidad obras contrataciones organización servicios es decir

inversión y luego la universidad como universidad que es estará sometida a los postulados a las leyes a los requisitos de cualquier universidad en relación con lo que sean su actividad económica a cualquier universidad no podrá funcionar como una mercantil desde luego tendrá que funcionar como una universidad así que hay que reconocer no hay que hablar tan ligeramente y lamentablemente lo hizo la rectora de la universidad del país vasco en la comisión de educación en relación con el ánimo de lucro como descalificador de la nueva universidad y no es así usted sabe que no es así si es una universidad tendrá que cumplir

de las universidades y yo creo que ahí hay que ser bastante serio y en ese sentido esperamos que la andadura

que el proceso fuese rápido que se aprobase cuanto antes para que la universidad echase en marcha cuanto antes porque hasta que no esté aprobada la ley no lo puede hacer pero bueno en cualquier caso

para la reinversión de lo que esa universidad consiga la reinversión en el propio desarrollo de un proyecto tan importante como este como lo fue en su día deusto o mondragon que también tuvieron sus comienzos y sus comienzos supongo que con sus dificultades y también tuvieron que invertir y también tuvieron

y volver a reinvertir y a desarrollar el proyecto de universidad y lo que está claro y en lo que tampoco se puede desconfiar

es que este proyecto universitario se asiente además en una experiencia educativa de otra comunidad autónoma

una experiencia educativa en una comunidad autónoma o sea que no se puede desconfiar de eso al final confiar pero

es en una realidad empresarial en una realidad empresarial y eso también no es bueno porque es una realidad empresarial muy anclada

es decir que está íntimamente conectada a la sociedad

íntimamente las empresas y las sociedades que componen esta entidad promotora están íntimamente en el corazón

es una garantía más de que va a haber seriedad de que va a haber suficiencia de que va a haber compromiso en relación con el desarrollo de

y está claro que se avanza en nuevas titulaciones

hemos hablado de deporte salud nuevas tecnologías inteligencia artificial estamos hablando de conceptos

muy desarrollados o sea que yo creo que son materias importantes y que justifican también una universidad especializada no se puede venir a descalificar que esto no es una universidad que esto es

y lo demostrará y desde luego también habría que recordar cuando se habló de las matrículas que también el promotor quien compareció

pero también habló de un sistema y una política de becas en relación con la universidad o sea que en ese sentido usted dígalo todo también porque también en ese sentido se habló de esas cuestiones bueno estas son las cuestiones que nos hacen desde luego nada partidarios de la enmienda de totalidad votaremos en contra y lo que deseamos es que

lo económico pero sí el hecho de colaborar en lo educativo para que esta universidad forme parte engrandezca aún más el sistema universitario vasco muchas gracias

eskerrik asko lo primero agradecer al señor carmelo barrio que haya expuesto

de oposición a una enmienda de totalidad y además yo creo que ha hecho una

el señor barrio nosotros nos oponemos a la tramitación del proyecto

nosotros y nosotras no podríamos decir nada y no estaríamos diciendo nada si este centro se estuviera creando como dice que sería más adecuado la mayoría de los expertos que han pasado por este parlamento

de que no haya una universidad privada que ese es otro debate y posiblemente

una universidad o no obviamente este es su modelo aquí se va a reconocer uno ustedes en madrid en los últimos años han reconocido trece universidades privadas que eran

que nadie está negando la calidad de esa formación yo

toda esta información no se tiene pero si se han escuchado las comparecencias en ningún momento desde nuestro grupo parlamentario nos hemos metido con

de formación superior y de calidad nadie está diciendo nada el paso de reconocer una universidad que pueda emitir títulos oficiales de forma propia es un paso que se tiene que tener en cuenta en la legislación vigente y los objetivos que tenemos en el sistema vasco universitario a mí me sorprende

a la legislación vigente de que tenemos un sistema vasco universitario definido que tiene una planificación que tiene unos objetivos que tiene un arraigo territorial social económico como el que usted citaba que podía tener

que no lo tiene usted hablaba de las universidades de cataluña pero es que son tres centros adscritos a otra universidad de cataluña no estamos hablando

abrir como centros adscritos por supuesto nadie lo niega y usted hablaba de la oferta ciencias del deporte se estudia con mucho prestigio además con un campus de araba potente que podríamos reforzaren la

y el tema de videojuegos y nuevas tecnologías las tres universidades están trabajando en temas relacionados y además el propio informe

privada a nuestro sistema vasco universitario pero presente aquí

claro usted decía usted es un catastrofista y ya todo lo que huela a privado pues no no nosotros hay dos universidades privadas sin ánimo de lucro en euskadi que yo sepa los centros concertados y las ikastolas son centros sin ánimo de lucro

el sistema educativo con reconocimiento y estamos introduciendo el lucro en la enseñanza superior no tiene nada que ver yo creo que no hacemos ningún bien si mezclamos esos debates la información

toda la información que estuviera en manos del departamento de educación yo sé que usted defiende

todo el trabajo del gobierno porque está de acuerdo con el proyecto si no seguramente estaría de acuerdo conmigo

le pasaron toda la información que es la que ha llegado en el mes de julio

el sentido de nuestro rechazo a la tramitación de este proyecto de ley porque

los requisitos fundamentales para ser una universidad y ojalá

de alguna manera también vamos a ser partícipes en este parlamento el gobierno y el conjunto de la sociedad vasca y alavesa y en ningún momento esto sí quería

hemos descalificado el proyecto hemos analizado el proyecto en base a la legislación vigente eso es lo que hemos hecho sin ningún tipo de

podría haber centrado solo mi intervención en la última parte en el modelo de enseñanza superior y lo hemos centrado en la legislación y lo que cumple o deje de cumplir por tanto

de enseñanza superior de calidad centrado y arraigado en el territorio en este caso en euskadi y ajeno a modelos

de madrid creo que este proyecto tiene que ser devuelto al gobierno eskerrik asko eskerrik asko martínez zatón erantzuteko barrio jauna popular ciudadanos jauna zurea da hitza sí
gracias presidenta desde el escaño con su permiso brevísimamente y no

parte de la exposición de la enmienda a la totalidad bueno ahí están yo no voy a reiterar los que yo he hecho en relación con la defensa de la necesidad

con el gobierno su iniciativa yo me ha pedido que entienda

sí lo que entiendo es el rechazo de su grupo lo entiendo pero lo entiendo por sus motivos ideológicos no y no por

seguir avanzando en la colaboración público privada a todos los niveles en esta sociedad yo creo que lo engrandece el hecho de una maquinaria bien engrasada que lo público y lo privado cumplan con las leyes pero que desarrollen riqueza

nuevas titulaciones o nuevos ámbitos educativos como el universitario y desde luego bien tutelados por la administración en lo que es un reto un reto y además un compromiso y una responsabilidad de educar a jóvenes su etapa universitaria

vigilantes y sabiendo pero en este momento lo que hay son compromisos para felicitar

por esa posibilidad de inversión por esa posibilidad de engrandecer como decía antes el espacio universitario vasco que es lo que entendemos va a hacer la
universidad euneiz muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

gracias señora presidenta bueno muy brevemente decir que en

para ampliar la oferta de formación universitaria no solo para la sociedad vasca sino también para cualquier persona que quiera realizar sus estudios entre nosotros entendemos que

entre universidades públicas y universidades privadas podemos ha desarrollado aquí toda su artillería esa en la que la iniciativa privada es lo malo y lo público es sinónimo de crecimiento de igualdad y de justicia y esto no es real entendemos que con ello buscan el control

y el sometimiento de la mayoría sin oportunidades sin diversidad y sin competencia algo en lo que estamos totalmente en contra por tanto bienvenida sea euneiz

a muchas otras de éxito además en la unión europea bienvenida una universidad que genera más riqueza en vitoria en álava y por ende en el país vasco ahora solo nos queda confiar en que euneiz disponga de tiempo suficiente para adecuar su oferta formativa a las exigencias del nuevo decreto de universidades

únicamente decir que el bienestar señores de podemos no es público ni es privado es simplemente la colaboración entre lo público y lo privado

y de evitar lo que en muchos casos pueden considerarse simples motivaciones políticas creo que aquí estamos analizando un proyecto de ley en cuya tramitación

comparecencias que se produjeron es cierto que existían posiciones encontradas de los distintos comparecientes también se les hizo ver por parte

corregidas y yo mismo les plantee a los representantes de euneiz

dudas con la legislación actual en el país vasco sobre el cumplimiento de todos los objetivos y que en cualquier caso la previsible modificación de la normativa estatal del decreto ya publicado de universidades haría imposible si no había cambios que se pudiera dar el visto bueno

de la devolución de este proyecto porque entendemos que se abre ahora un espacio para que se puedan ir acomodando todas aquellas disposiciones requisitos y condiciones que la nueva legislación estatal establece

las adecuaciones necesarias por parte del actual proyecto de ley por eso nos ha parecido más interesante darle cauce en el parlamento que es

y después evidentemente seremos muy exigentes también con las modificaciones que se establezcan en este sentido con el grupo nacionalistas y socialistas hemos presentado una batería de enmiendas que lo que vienen a establecer es el cauce necesario

que la nueva legislación de carácter estatal establece y pueda llevar a cabo si se cumplen la puesta en marcha de este proyecto de universidad nuestra intención ha sido solo esa independientemente de las valoraciones políticas que a cada uno nos pueda

peor o rematadamente mal que sea una iniciativa privada la que ponga este asunto encima de la mesa no creo que

se ha presentado un proyecto de ley por parte del gobierno existe la posibilidad no la obligación de adaptar este proyecto de

darles la oportunidad de que esto pueda llevarse a cabo

de la entidad promotora de este proyecto el que sean capaces o no de cumplir la legislación que actualmente está vigente eskerrik asko pastor jauna

astean y aquí me voy a detener un momento porque creo que es

al proyecto de ley de euneiz y es que cuando los promotores

se dirigieron al departamento de educación en noviembre de dos mil dieciocho lo hicieron como no podía ser de otra forma ateniéndose a la normativa que estaba en vigor y entre ellas al real decreto

el reconocimiento de universidades en este caso a nivel estatal

normativa que también estaba en vigor prácticamente dos años y medio después cuando en el consejo de gobierno del gobierno vasco el pasado dieciséis de marzo se aprueba el texto del proyecto de ley que se remite a esta cámara para su tramitación parlamentaria

cuando se producen en el seno de la comisión de educación

tribuna hasta el veintisiete de julio cuando se publicó el real decreto

en el periodo de enmiendas una fecha en la que nos encontrábamos en el periodo de enmiendas dado que elkarrekin podemos había solicitado una prórroga

y en estas circunstancias sobrevenidas y a diferencia de la postura del grupo que propone hoy la enmienda a la totalidad vimos que teníamos una buena oportunidad para reencauzar la ley y dotarla de todas las garantías legales y jurídicas pertinentes

enmiendas para asegurar que esta ley no entre en choque no entre en colisión con ninguna otra normativa actual y que el proyecto pueda continuar su tramitación y la universidad pueda continuar su camino y es que será posterior y de la aprobación en esta cámara cuando euneiz tendrá que cumplir con toda la normativa y todos los requisitos que recoja la normativa que les sea aplicable y de todo ello será garante como lo ha sido a lo largo de todo el expediente el departamento de educación

de otra forma por todo ello hemos votado que no a la enmienda de elkarrekin podemos a la enmienda a la totalidad porque no queremos poner más palos en las ruedas no queremos ralentizar aún más este expediente y queremos avanzar y queremos ayudar a ello y en este

en esta oportunidad vemos eso una oportunidad para ayudar y tratar de que

y sea una oportunidad y tratar de fortalecer todo el sistema tratar de cohesionar aún más el territorio histórico de araba y la ciudad de vitoria gasteiz y en eso estará siempre nuestro grupo no busquen por tanto enfrentar a esta universidad con ninguna otra con la universidad del país vasco ni con ninguna

y además de manera importante el enriquecimiento y el fortalecimiento de todo el sistema besterik gabe eskerrik asko

presidenta señorías la protección de los animales en este caso que tratamos

de las instituciones en dos mil diecinueve ya fue impulsada esta iniciativa que se paralizó con la convocatoria electoral y se demoró con la pandemia hoy volvemos con ella a esta cámara para dar curso a una proposición que en breve queremos que sea ley

de respeto protección y bienestar que se viene reclamando y regulando para los animales la convivencia con los animales va más allá del capricho o la moda y constituye un ejercicio de responsabilidad en la tenencia y cuidado

según se les trate y por ello merecen respeto y atención correcta la legislación europea avanza en esta dirección y la legislación vasca

en la actualidad a pesar de estos esfuerzos y consideraciones también se producen episodios de maltrato de crueldad de mutilaciones para beneficio de intereses humanos

exige avanzar en la protección jurídica en euskadi se viene produciendo legislación en este sentido desde hace décadas y ahora toca actualizarla y mejorarla

en el tiempo futuro ir avanzando y servir de complemento junto con las ordenanzas municipales a la mejora de la protección a los animales de compañía y de otras especies que no estén amparadas por normativa específica en esta proposición establecemos disposiciones sobre

trato transporte o comercio de animales abordamos las obligaciones de las personas titulares o responsables de los animales

y de identificación de animales medidas de protección de animales extraviados o abandonados los castigos a estas conductas y la prohibición de sacrificios

se mejora la relación entre asociaciones de protección y defensa animal con las administraciones y se crea un consejo interinstitucional de bienestar y protección de los animales

el registro general de identificación de animales de compañía y el régimen sancionador ante el maltrato con un severo endurecimiento de sanciones

la proposición ha contado cuenta con la participación en ella de ayuntamientos y diputaciones termino

no critican no hacen preguntas son agradecidos leales afectivos son buenos comunicadores van ligeros de equipaje no contaminan con el coche no se hipotecan en los bancos no están obsesionados con el móvil

ni beben sin sed ni hablan sin tener nada que decir como hacemos los humanos y con tantas virtudes

esos modos nuevos son especialmente visibles en la relación entre seres humanos y el resto de especies animales especialmente los domésticos habiendo surgido nuevas sensibilidades que pretenden acercarnos al resto de seres vivos aunque como casi siempre que hacemos una ley

pero eso casi seguro que es inevitable mientras perros o gatos no tengan la capacidad de redactar y aprobar las leyes que traten sobre ellos

se presentó en esta cámara lo apoyamos porque entendimos que aquel proyecto venía a consolidar de una manera certera y digna

a su admisión a trámite pues bien aquella proposición de elkarrekin podemos nos constaba que se había trabajado con asociaciones sectoriales

cuando íbamos a comenzar el trabajo de comparecencias el parlamento fue disuelto

nos planteamos el grupo socialista y nosotros retomarla en tanto ya estaba prácticamente elaborada lógicamente

y nosotros nos pusimos a trabajar en la parte que faltaba y analizamos en profundidad su contenido con las administraciones que van a tener que asumir una gran carga de trabajo con esta ley especialmente ayuntamientos y diputaciones además del propio gobierno vasco estos meses nos hemos dedicado a eso

que han sido complejos y difíciles por momentos y en los que todas y todos han tenido que dejar

en definitiva creo que se requería esta pequeña historia para contextualizar esta proposición pues el resto sus contenidos y el porqué de la misma los conocen y ya se debatieron en su día en esta cámara no obstante como ya les he dicho no puede obviarse que esta ley avanza respecto al anterior

sensibilidad social realmente han cambiado también sabemos que para unos esta ley se quedará corta a otros les parecerá una exageración

y ni el talibanismo respecto a una visión del animal doméstico prácticamente como ser humano

tienen cabida en este proyecto de ley hemos intentado buscar puntos medios adaptados a lo que creemos es la nueva visión social de los animales domésticos

porque fueran arriesgados y vuelvo a repetir siempre hemos considerado el ingente trabajo que volcaremos con esta ley en las administraciones solo si consideramos que el regia el registro público de animales de la administración

deberíamos comenzar a ser conscientes de la dimensión del asunto

irresponsablemente nos comportemos socialmente con tanta facilidad nos hacemos con animales y con tanta facilidad nos deshacemos de ellos

que deberíamos regular y así esta ley lo que pretende es actuar de dinamizadora de una nueva concienciación y toma de responsabilidad para que cuando cualquier ciudadana cualquier ciudadano decida cuidar un animal

y esta ley pretende regular el tema de tal manera que cada vez que se adquiera un animal doméstico se haga con todas las consecuencias de vivir con él y cuidarlo

solo con ese compromiso social habremos dado un salto de gigante en la protección de animales domésticos

fundamentalmente a los ayuntamientos y también a nuestros impuestos de tener que hacerse cargo de lo que algunas personas les gustó pero ahora ya no les gusta

en definitiva y lo digo con total sinceridad lo mismo que la ley de mil novecientos noventa y tres la precedente a esta se logró aprobar por unanimidad

entra en este parlamento con la vocación de repetir aquella posición de los grupos porque entre otras cosas entendemos que este proyecto puede ser además

en unos momentos de importantes discrepancias y a veces descarnados debates hay agentes sociales que ya han señalado que esta ley va muy allá otros

y sabemos que nuestro grupo en nuestro grupo que acertar con todos en un tema de sensibilidades tan dispares y tan distantes es enormemente difícil más cuando es un tema

todo el mundo por eso desde el primer momento nos hemos planteado intentar hacer una ley que satisfaga a una mayoría ciudadana la cuestión es lograr saber dónde está la opinión de esa mayoría y sabemos que eso exige indagación imaginación

decisión y que nadie venga diciendo que sabe dónde está esa mayoría

que todavía no lo sabemos es un tema de fácil opinión al no suponer mayores compromisos está de momento despolitizado y los que opina más son las asociaciones animalistas

y ellas no representan la opinión de la mayoría social

con todo tipo de asociaciones con diversos intereses queda continuar conversando con las administraciones que van a gestionar esta ley pero sobre todo queda mucho intercambio entre los grupos parlamentarios para lo que inicialmente pido

la nuestra sepan que está garantizada si todos somos capaces de llegar a una síntesis y abandonamos maximalismos estoy seguro que llegaremos a buen puerto eskerrik asko

presidenta señoras señores parlamentarios buenos días isiltasuna mesedez hemos votado favorablemente

tiempo que consideramos necesaria la actualización de nuestra legislación en la materia pero no porque entendamos que el texto propuesto o la iniciativa sean los mejores

otra proposición de ley con este mismo objeto en buena parte con el mismo contenido lo hicimos dispuestos a aceptar

y de enmiendas pero el gobierno se opuso a su tramitación es decir se opuso a la toma en consideración dijeron entonces que la ley vigente era una ley integral que no era precisa una norma para animales de compañía

ocupaba de temas menores y en cambio no hablaba por ejemplo

han pasado tres años y podían haber pasado dos cosas una que el gobierno mantuviera su criterio y supusiera la toma en consideración como hizo en dos mil dieciocho otra que el gobierno hubiera cambiado de opinión

de firme en el tema y nos remitiera un proyecto de ley acompañado de los correspondientes informes pues bien ni una cosa

un proyecto de ley se han limitado a pasar a los grupos que apoyan al gobierno este texto que hoy tenemos en consideración

ningún análisis ningún reconocimiento del error de hace tres años tan solo una proposición de ley pero tres años después conclusión

tres años ni siquiera han abordado las cuestiones

y defensa de los animales de compañía ni un artículo dedicado

que tanto les preocupaba entonces si algo ha quedado claro es que dijeron no porque no a la toma en consideración en el dos mil dieciocho

elegida porque el gobierno dispone de más medios para plantear un debate en profundidad en torno a cualquier proyecto de ley en una ley como esta que tiene alguna complejidad

de desear una tramitación más elaborada

puede impulsar la oposición en todo caso de ahí nuestro voto favorable

de mil novecientos noventa y tres ni tampoco la sensibilidad social

mayor que hace tres décadas y desde entonces son muchos los cambios en las normativas sectoriales buen reflejo de ello es todo lo relativo al bienestar

o las sucesivas reformas del código penal que tipificaron como delitos primero el maltrato animal y después en dos mil quince el abandono y otras conductas agravando las penas

que la nueva ley hacía falta parecía claro en dos mil dieciocho y era ya inevitable nosotros décimos que necesitamos una ley integral de protección animal que respetando las normativas sectoriales de cada especie sea a la vez una herramienta jurídica útil una ley

aragón baleares y que también tendrá cantabria por ejemplo

pero en euskadi no con la propuesta presentada por ejemplo se podrá seguir manteniendo a perros aislados

impunemente al no establecerse la prohibición de esta práctica pero

nos parece que el texto es insuficiente en algunos aspectos su posposición deja huecos que nuestra proposición de ley cubría y por tanto trabajaremos vía enmienda

esperamos que los grupos que apoyan al gobierno titulares de la iniciativa no pretendan con su mayoría impedir aportaciones a un texto que está mereciendo

nosotros en todo caso trabajaremos por el acuerdo muchas gracias eskerrik asko larrea andrea elkarrekin podemos ezker anitza soto jauna zurea da hitza

egun on buenos días ya que se ha mencionado

hubiese sido oportuno bajo nuestra consideración que se hubiese parecido en algo porque la verdad es que es una versión bastante esclerotizada de lo que fue

básicamente por una razón fundamental y que de hecho la señora larrea ya ha planteado y es que la proposición actual se limita exclusivamente a los

integral de la cuestión como sí la tenía la propuesta que hizo nuestro grupo la legislatura anterior y que efectivamente concitó

el pnv y nuestro grupo parlamentario y la realidad es que en fin ese acuerdo que la legislatura anterior parece ser que se iba a materializar pero

no ha sido posible por la naturaleza del texto que plantean los dos grupos que sostienen al gobierno y además es que pensamos que

es una clara oportunidad perdida para avanzar en la protección de los animales se ha mencionado la legislación del noventa y tres de mil novecientos noventa y tres y

tres décadas y consideramos que mucho ha cambiado la sociología y también la mentalidad en relación con la protección animal

en pocas cuestiones mejora la proposición de ley de los grupos que sostienen al gobierno con respecto a la del noventa y tres que sí hacía

propuesto la ley del noventa y tres plantea la protección no solo a animales domésticos sino también domesticados salvajes en cautividad o dicho de otro modo

animal que dependa de los seres humanos para subsistir creemos que ese debiese ser el planteamiento y en esa línea actuaremos en el trámite de la proposición mediante enmiendas parciales y en caso de que

partidos que sostienen los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno en su posición de no abordar esta cuestión

y no nos vale porque creo que se ha mencionado de pasada que se diga que hay normas sectoriales que

cuestiones ligadas a la ganadería o a la caza porque no es verdad hay cuestiones

que en esas normativas sectoriales no se abordan y que debiesen bajo nuestra consideración figurar en una normativa de estas características

de ley que ahora mismo estamos planteando si va a entrar en trámite va a haber cuestiones que no van a poder ser abordadas o que no se abordan para empezar esta ley permitirá el comercio ambulante de caballos

como premios esta ley permite salir indemnes a quienes promueven peleas entre carneros o graben y difundan actitudes entre animales esta ley lo ha dicho la señora larrea permitirá mantener atado a un perro veinticuatro horas al día los trescientos sesenta y cinco días del año esta proposición de ley permite que se pueda sacrificar todo lo que consideremos plagas urbanas un término absolutamente ambiguo

un perro un gato o un hurón que vivan en algún domicilio podrá ser considerado

sacrificar y matar a toda una colonia de gatos por poner un ejemplo

y no optar por otras técnicas más éticas como la

una ley integral de bienestar animal que no se ponga la excusa de otras normativas sectoriales para no plantearlo de manera integral y en ese sentido

lo que plantearemos será enmiendas parciales que la mejoren sustancialmente siguiendo el hilo de lo que ya en la legislatura anterior concitaba un acuerdo y esperemos que en esta también

tras el intento del grupo popular fue elkarrekin podemos el grupo que en junio de dos mil diecinueve presentó un texto que tal y como se ha adelantado

y fue admitido a trámite en esta ocasión se admitió a trámite porque según el gobierno en la iniciativa proponía aspectos positivos en el ámbito de la protección y el bienestar animal de hecho

matices que para muchas personas podrían pasar desapercibidos pero que cambian la proposición y su ámbito de aplicación de manera esencial

apta para su tramitación y se nos ha traído un texto igual en la forma al de elkarrekin podemos pero mucho más restrictivo en el fondo como el del grupo popular un texto que deja en el limbo muchos aspectos que sí regula la ley actualmente en vigor desconocemos a qué obedece este cambio de criterio

ni menos ni menos ni más un compromiso y una voluntad lehendik ere izan dena ustez behintzat

ez transferentzia era osoan planteatuko denaren bermerik ere ez lo recogían bien los medios

el gran escollo que distancia a los gobiernos vasco y español la transferencia del ingreso mínimo vital podría estar en vías de solución podría

igual sí igual no ninguna garantía tampoco de las palabras de escrivá este martes en el senado ante la pregunta de nuestra compañera la senadora idurre bideguren el ministro dijo que ni sí ni no ni todo lo contrario

deslizó que incluso que sería adecuado pero señaló también que bueno que lo que se pedía supera lo acordado

había ido más allá que tiene que haber modificaciones legales en fin que aquí no hay nada cerrado ni garantía alguna

negoziaketan jaurlaritzak duen posizioari presentamos esta iniciativa entendiendo que en esa negociación que se tiene que dar con el gobierno del estado un mandato parlamentario refuerza la posición del gobierno vasco en un tema tan importante y prioritario

deberíamos utilizar con más frecuencia para reforzar nuestra posición negociadora como país en temas que consideremos prioritarios y estratégicos

o para luego no lamentarnos como lo hacía ayer el consejero azpiazu por el reparto de los fondos europeos y miren si no lo hemos intentado horregatik

baliatu behar dugula es un acuerdo de mínimos que esperamos que sirva de impulso definitivo en la posición que tiene el gobierno vasco en la negociación de un tema tan importante y que puede ayudar a convertir una prestación de impacto limitado

o denegadas o desestimadas o desistidas o archivadas y según se nos señala el motivo de las denegaciones siempre es el incumplimiento de alguno de los requisitos recogidos en la norma actual no es que no se diera una situación de necesidad sino que no se cumplen las condiciones que se ponen no y esto en sí mismo

y diría que la crisis sanitaria también ha puesto a prueba la adecuación y la fortaleza de nuestro sistema de garantía de ingresos

porque lo importante no es la transferencia en sí lo importante es para qué queremos gestionar para qué queremos la transferencia del ingreso mínimo vital

bizkaia y gipuzkoa en una ventana de oportunidad para proteger y mejor y para responder a las necesidades acuciantes que nos está dejando por ejemplo esta pandemia para nosotras el ingreso mínimo vital es una ventana de oportunidad

y políticas de protección y es una oportunidad para transformar el diseño futuro de nuestras políticas de garantía de ingresos y sobre todo es una oportunidad para invertir en la reducción

y su intensidad en definitiva lo que decía antes es una oportunidad para proteger más y mejor eta horrela jakinarazi genion por cierto urkullu lehendakari berari ere

lejos de hacer que el ingreso mínimo vital se integre en nuestro sistema de protección

es más como una prestación integrada en el régimen de la seguridad social estaría ya incluida en ese famoso calendario que tienen los gobiernos

y de la comunidad autónoma para la negociación de transferencias por cierto a iniciativa de euskal herria bildu no ahora lo único que pasaría es que se adelantaría

esa prestación no sería más y quizá hay una parte

en este tema en que en esta transferencia debería ser la antesala el paso previo de la transferencia del resto de políticas pasivas de empleo y la seguridad social en general

en este momento se esté limitando a la mera gestión es muy preocupante eta guk esan dugu orain baino lehen berrogei urte beranduago kudeaketa hutsarekin ez gara konformatuko

y hay que subrayar también que este es un embrollo

que tiene unas afecciones muy importantes no es un embrollo

en toda esta situación es bastante caótica oso zaila da bi prestazioen uztartzea

y así hemos visto cómo el estado ha empezado a pagar las prestaciones reconocidas que en ocasiones han llegado

y hemos visto cómo lanbide ha activado la solicitud de cobros indebidos a plazos pero devoluciones

imposible e incluso quizá lo que resulta más grave no hemos visto que aquellos que sin ser anteriormente perceptores de la renta de garantía de ingresos ahora que lo son

en los que no eran perceptores tienen que devolver la cuantía a lanbide en fin es un caos que no nos podemos permitir mantener más tiempo

eta adostea baina hori bere horretan eta ikusi dugu kontu honekin ez da nahikoa creo que lo ocurrido con el ingreso mínimo vital es un ejemplo claro y muy práctico y muy gráfico de lo que venimos viviendo o

o de erosiones silenciosas verdad señora garamendi

con todos sus problemas y sus deficiencias el estado decide poner en marcha el ingreso mínimo vital y pese a que en términos generales tiene poco impacto

es más garantista de repente nuestro sistema queda subordinado a la prestación del estado y nos convertimos de un día a otro en una sucursal o en una ventanilla como decía

al principio como apaño pero luego el embrollo va a más el tema se complica y hasta cuándo va a ser esa situación

hasta que el gobierno del estado quiera y mientras se organiza un lío

afectadas y pérdidas muchísimas personas en este caso miles de personas beraz instrumentu horietaz aparte argi geratzen da bestelako

a las cotidianas a las cosas del comer que ahora toca ampliar y consolidar derechos como si fueran dos caminos excluyentes pues acordarnos de todo este embrollo acordados de todo este embrollo en torno al ingreso mínimo vital de todos los escollos

que se ha generado de la afección que eso tiene en las personas y en la ejecución de sus derechos acordaros de eso un ratito y

nuestro grupo parlamentario apuesta tal y como se refleja en la transaccional por profundizar en el autogobierno y en esta cuestión concreta desde luego

con más razón y con más esfuerzo consideramos que es necesario agilizar en lo posible la transferencia de este recurso que es

en el marco del estado y que en euskadi en todo caso lo que supone es una oportunidad de refuerzo de lo que ha venido siendo el escudo social propio la situación de desprotección que vivimos en estos momentos tras la pandemia la situación económica la desigualdad agudizada los indicadores de pobreza

en la alerta de lo necesario de un sistema de escudo social que no deje realmente a nadie atrás

desde diferentes grupos parlamentarios y desde el tercer sector necesita declarar reformas y de un esfuerzo por acometerlas evidente ya que desde luego no ha servido para atender en su integridad el nivel de desprotección que vivimos como sociedad el lehendakari

respecto al ligero descenso del número de personas en pobreza real severa en la comunidad autónoma lo que no nos contaba es que existen otras cifras que se esmeran en ocultar aumento del número de personas en riesgo de pobreza relativo en torno a cuatrocientos mil personas aumento del riesgo de pobreza grave

personas aumento de la pobreza infantil casi el sesenta por ciento de la población en situación de pobreza son hogares con menores de catorce años la pobreza infantil

en los dos últimos años hasta alcanzar a un once coma siete por ciento de la población menor de catorce años el gobierno vasco lleva desde dos mil doce

mientras en su encuesta de pobreza y desigualdades admite que un tercio de la población como bien

de euskadi se encuentra con serias dificultades para llegar a fin de mes tan necesaria como la transferencia de autogestión del ingreso mínimo vital es la gestión eficaz transparente y social actual una gestión criticada desde la calle hasta las instituciones por la alta burocratización el endurecimiento de los requisitos de acceso la obsesión por el control

inexistentes así pues décimos sí a la transferencia integral del ingreso mínimo vital pero con el objetivo explícito de poder reforzar y así viene también en la transaccional

nuestro propio sistema de protección social desde la obligación como poderes públicos de responder al derecho subjetivo de toda la ciudadanía vasca una renta que garantice una vida digna qué mejor oportunidad de hacer muestra del autogobierno de euskadi que ir más allá en el escudo social desplegado para hacer frente a la post pandemia precisamente en el uso de una medida tan importante

nos parece bien poner el foco en el desarrollo del autogobierno pero sin perder de vista la reflexión que conllevará la gestión de dos prestaciones que a día de hoy y también se ha dicho está conllevando innumerables problemas y también el para qué en nuestra opinión y así viene recogido en el texto

transferido en su integridad debe servir para la ampliación del alcance y garantía de dos derechos fundamentales el derecho a unos ingresos que posibiliten una vida digna y el derecho a la inclusión nuestro grupo entiende que la transferencia íntegra del ingreso mínimo vital

compartido lo mismo que lo ha sido desde el ejecutivo del estado la puesta en marcha de este instrumento pero siempre hemos defendido que lo mismo que ha sido un hito en el estado lo era y es aprovechar esta oportunidad en euskadi y asegurar que el ingreso mínimo vital mejore el sistema vasco de prestaciones sociales

para que este acabe efectivamente con la pobreza partamos de lo que ha sido una prestación como la rgi efectivamente en muchos casos desde luego mejor

que el ingreso mínimo vital planteemos el ingreso mínimo vital como una oportunidad de refuerzo

nuestra formación nuestro grupo parlamentario además cree que en el momento actual de reforma de la ley del sistema vasco de garantía de ingresos y para la inclusión se abre una oportunidad

que desde una perspectiva de género y de blindaje de derechos avance en la individualización la no condicionalidad y universalidad

la llegada de la transferencia del ingreso mínimo vital no puede en ningún caso y vamos a estar vigilantes para que eso no ocurra en una retirada o merma en alguno de los recursos destinados a la rgi o en el sistema de prestaciones

de euskadi consideramos que es importante que la transferencia integral del ingreso mínimo vital se haga desde la garantía de que la gestión de este pivotará sobre cuatro ejes fundamentales los mismos que diversas organizaciones reclaman como imprescindibles para su inclusión en el proyecto de reforma de rgi el enfoque de derechos

y la accesibilidad universal sobre todo la accesibilidad en los procesos de información y comunicación de la gestión de ambas rentas teniendo en cuenta el avance de la digitalización y de las alertas que sobre esto mismo nos trasladaba el ararteko hace unas semanas en su informe

y las relaciones de la ciudadanía por terminar nuestro grupo parlamentario se congratula del acuerdo consideramos que el ejercicio y

que vamos a hacer aquí pues una mayoría amplia

con la solicitud de la transferencia íntegra del ingreso mínimo vital es una buena noticia y esperemos que desde luego esta llegue cuanto antes eskerrik asko

yo creo que como casi con todas las cosas puede verse desde diferentes prismas y además dependiendo de la actitud de cada uno de nosotros más positivas o más negativas yo no sé si será por pragmatismo por experiencia por optimismo antropológico por una mezcla de las tres

podemos hablar de varias buenas noticias para el conjunto de la ciudadanía vasca y yo no voy a empezar por la última que es que tenemos un acuerdo una enmienda transaccional los grupos enmendantes y el grupo proponente voy a empezar por el principio por la primera y es que todos los representantes de los vascos en el congreso de los diputados hace año y medio avalaron

aquí no vamos a discutir de si es necesario o no todos lo compartimos por lo que nos toca a los socialistas lo llevábamos ya en el programa electoral en el año

poner en marcha no se le puede agradecer nada a la pandemia pero es verdad que la pandemia ha acelerado esta decisión la segunda de las buenas noticias que podemos trasladar a la ciudadanía vasca

creemos necesaria la transferencia del ingreso mínimo vital y fíjense si se paran a mirar un poquito la tradición parlamentaria no abundan demasiado

esta coincidencia es muy importante tercera buena noticia y que además a los socialistas vascos nos genera bastante satisfacción

de los representantes aquí sentados que esa transferencia se tiene que concretar

de ingresos y esto para nosotros es importante porque lo introdujimos expresamente en el acuerdo

en un modelo diseñado por el departamento de la vicelehendakari idoia mendia porque esto nunca fue una pose esto fue es y será una convicción por concepto de nuestro autogobierno lo decía alguien que ha intervenido antes que yo sí pero más importante

y pensando en lo que esto supone para las personas perceptoras y también para los trabajadores y trabajadoras de lanbide hoy con la encomienda de gestión no se entiende muy bien qué es esto y además a qué ventanilla tienen que acudir

ponerlo fácil y en ello estamos no hay otra opción nosotros no tenemos un plan b y la vicelehendakari fue muy clara desde el principio

un grupo de trabajo para ver la encomienda trasladó de primera mano

era la transferencia íntegra posteriormente se dio cuenta de esto al lehendakari y desde entonces trabaja de forma coordinada con la consejera garamendi

culminar el acuerdo y mi grupo está confiado en que vamos a conseguir cerrar ese traspaso y hacerlo en los términos que hemos dicho que comparten las consejeras

parlamentario hay una cuarta buena noticia que son las señales que se envían por parte del gobierno vasco y por parte del gobierno de españa la reunión del pasado viernes con la

con voluntad de avanzar y de acordar y también las declaraciones del propio escrivá a las que se hacía anteriormente

donde nos dijo que nos pondremos de acuerdo y que tenemos que ir a un modelo de ventanilla única porque lo que nos debe importar a todos

una ventanilla es el camino que tenemos que recorrer y encontrar el marco legal por el cual eso pueda materializarse este escenario conjunto que les acabo de contar a los socialistas vascos nos hace plantearnos que estamos por el buen camino con la satisfacción de que esa transferencia se acabe concretando

de garantía de ingresos porque se lo he dicho antes no era una pose era y es una convicción sobre cómo debe ser

el que queremos para el futuro partiendo del sistema de mayor éxito de protección que hay en españa y que garantiza a toda la ciudadanía una renta determinada cuando cumple unos requisitos una renta subsidiaria

que pueda tener esa persona titular del derecho y si me permiten es importante aclarar también que hoy no estamos discutiendo el modelo futuro eso le corresponderá a esta cámara sacarlo adelante cuanto antes mejor porque aquí también tenemos otra buena noticia

está realizando a tiempo sus deberes y son conocidos por todos nosotros en la réplica contestaré a algunas cuestiones de las que ha señalado el señor soto pero haciendo

en enero la vicelehendakari dio orden de inicio de la elaboración de la futura ley del sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión en mayo esa ley estaba redactada y presentada públicamente

y solo faltan los informes internos para que este parlamento la trabaje un proyecto que tal y como está comprometido en el programa de gobierno contiene un modelo

que llega con mayor intensidad donde hay menores y también donde hay mayores y que incluye mejoras aportadas en la pasada legislatura tanto por el tercer sector como por grupos

y deseo que todos aprovechemos la oportunidad para ser conscientes de que en nuestra mano estará seguir construyendo la euskadi social

los socialistas hoy nos quedamos con lo relevante una gran mayoría coincidimos con la necesidad de transferir el ingreso mínimo vital coincidimos también en que debe formar parte de nuestro sistema de garantía de ingresos e inclusión tal y como los socialistas vascos hemos defendido siempre

y confiamos en cerrar ese traspaso vamos por el buen camino y hay voluntad y por otra parte el departamento de trabajo y empleo liderado por la vicelehendakari idoia mendia

que contempla la nueva realidad del ingreso mínimo vital

para su debate por todos los grupos coincidimos en muchas cosas como ven y con la altura de miras que este asunto requiere

partido nacionalista vasco eh bildu y podemos a quienes quiero agradecer esta postura y especialmente al grupo

que lanza la última y más importante de las buenas noticias y es que todos tenemos por objetivo común reforzar nuestro sistema de renta de garantía de ingresos con el objetivo de hacer frente a la pobreza y la exclusión social

pues a ello nos emplazo tendremos tiempo gracias eskerrik asko rico jauna

la primera la necesidad de que se materialice esa transferencia de forma integral la segunda su preocupación

ley del sistema de garantía de ingresos al no poder reforzar nuestro sistema de protección social

a otras transferencias ideas que compartimos en gran medida nosotros en su día enmendamos su iniciativa

usted planteaba en su justificación instando a su cumplimiento en dos áreas la primera área transferencia de imv instábamos a los gobiernos

y del estado a culminar cuanto antes el proceso de transferencia del ingreso mínimo vital tal y como está

a que se haga de forma integral instábamos en segundo lugar al gobierno vasco a reforzar el modelo de renta de garantía de ingresos

con el objetivo de fortalecer el modelo hoy firmamos este texto de transacción en el que vemos reflejada nuestra enmienda y nos alegramos del amplio

esas dos partes la transferencia en primer lugar creo que en esta cuestión es importante recordar cómo el veintisiete de mayo de dos mil veinte nuestro portavoz en el congreso aitor esteban

por el que se van a asumir en euskadi las funciones y los servicios correspondientes

deberá contener un concreto texto en una disposición adicional conforme al mencionado texto el gobierno del estado se compromete como ya se ha comentado a la transferencia del imv a través de los correspondientes acuerdos de la comisión

y se compromete a que el traspaso deberá tener lugar antes del treinta y uno de octubre de dos mil veinte el partido nacionalista vasco se compromete a votar

desde nuestra óptica este acuerdo sin duda pone una vez más de manifiesto la eficacia de nuestro partido en la defensa en madrid de los intereses de la ciudadanía vasca encauza jurídica y materialmente la implementación del imv

social a nuestra ciudadanía y apuntala el autogobierno vasco al reforzar la bilateralidad el gobierno del estado aprueba el real decreto ley

cumpliendo con el primero de sus compromisos al recoger estrictamente el texto pactado en la disposición adicional quinto del decreto el diez de junio de dos mil veinte el decreto se convalida

su compromiso el treinta y uno de octubre de dos mil veinte finaliza

la transferencia no se materializa en ese momento el gobierno del estado empieza

ha pasado casi un año desde ese primer incumplimiento y seguimos esperando es verdad es verdad que esta vez con un compromiso que arrancó la sailburu garamendi a la nueva ministra de política territorial isabel rodríguez en el encuentro que mantuvieron el pasado viernes queremos ver el vaso medio lleno queremos

y que la nueva ministra se ha activado en esta importante cuestión porque la pandemia primero las elecciones catalanas después la remodelación en julio

no se haya hecho efectivo en la fecha pactada nos quedamos con que va a llegar en breve y nos quedamos con que lo hará en los términos acordados es decir un traspaso

que respete el autogobierno y en este punto me gustaría destacar el posicionamiento compartido con el partido socialista de euskadi

que usted misma le realizó el pasado once de junio decía la sailburu el gobierno vasco garantiza el cumplimiento de su programa de gobierno este programa de gobierno incluye la transferencia íntegra del ingreso mínimo vital y eso concluía

cuya actitud nosotros nuestro partido ha cuestionado al entender que era un freno en toda esta negociación ahora entramos parece

ya no sirven más excusas la segunda parte reforzar nuestro modelo de protección

una gran parte de nuestro programa electoral referida al modelo de protección lo vemos reflejado

socialista en septiembre de dos mil veinte que es base del programa de gobierno que recoge el compromiso esencial de desarrollar mejorar y reforzar el modelo de renta de garantía de ingresos contemplando la nueva realidad del ingreso mínimo vital

ya que los sistemas de garantía de ingresos constituyen una de las características distintivas de los estados de bienestar de la unión europea y forman parte del núcleo

no puede decirse que las rentas garantizadas hayan sido capaces de erradicar por completo la pobreza y la exclusión social en europa es innegable el impacto positivo que tienen en este contexto el modelo vasco de garantía de ingresos resulta plenamente coherente

tras más de treinta años de desarrollo nuestro sistema se ha convertido en una de las principales

un éxito colectivo sin duda y un referente un modelo que ha sido capaz de prevenir y contener el crecimiento de la pobreza y la desigualdad en euskadi sin comprometer la competitividad y la capacidad de generación de empleo de la economía vasca de hecho es uno de los factores que explican la mejor posición socioeconómica comparada de nuestra comunidad y su capacidad para seguir

sin embargo el crecimiento en el número de las personas paradas de larga duración la falta de recursos de las personas migrantes la feminización del riesgo de exclusión

o la situación de las personas pensionistas con escasos recursos económicos son algunos ejemplos de los distintos factores que han contribuido al incremento del volumen de personas

se está viendo acentuada por el crecimiento de formas más precarias de empleo

con menor cualificación todo esto lo hemos podido comprobar más duramente durante la crisis sanitaria y socioeconómica provocada por la pandemia nos enfrentamos

en los próximos años y para ello y para ello tenemos que utilizar eficientemente todas las herramientas a nuestro alcance el imv es

por lo que debemos reforzar nuestro sistema de garantía de ingresos contemplando esta nueva realidad esto nos obligará a ganar en eficacia

con requisitos y obligaciones diferenciadas la sailburu mendia en la presentación de las líneas básicas de su departamento

política que tenemos los grupos parlamentarios de sentirnos protagonistas del refuerzo del sistema vasco de protección social nos decía

procuraremos acordar y en cualquiera de los casos actuaremos porque las circunstancias así lo exigen nosotros hemos hecho esta reflexión

el guante sailburu nuestra vocación de diálogo y acuerdo está intacta porque si de verdad queremos entre todos y todas reforzar el sistema tendremos que hacerlo desde el rigor y la serenidad alejándonos de la demagogia y el discurso fácil

hemos contado con un instrumento que ha evitado muchas situaciones de pobreza y ha facilitado la inclusión sociolaboral ahora tenemos que adecuar mejorar y reforzar para seguir siendo esa vanguardia si compartimos esto

tenemos una parte importante del camino recorrido estamos ante una inmensa oportunidad política que no podemos perder y aprovechando este buen momento como usted hacía que vivimos hoy alrededor de este acuerdo

perder esta oportunidad nuestro grupo parlamentario nosotras y nosotros asumimos ese compromiso eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora presidenta buenos días de nuevo a todos

y una vez más lo hacen aprovechándose de su mejor situación respecto al resto de las provincias españolas en calidad además de socio necesario para mantener en el poder al señor sánchez un estatus que además comparte no lo olvidemos con los señores del pnv que de momento ya han conseguido autonomía en la gestión del ingreso mínimo vital

en vox por supuesto estamos en contra de este ingreso mínimo vital en las condiciones en las que se han aprobado en este gobierno nos oponemos porque suponen un efecto llamada al desempleo crónico es decir un pan para hoy y hambre para mañana que conduce irremediablemente a la cronificación de la pobreza

no es la solución para quienes peor lo están pasando sí es cierto que puede ser un alivio temporal pero en ningún caso debe ser una ayuda permanente

ha hecho que muchos españoles ya no busquen trabajo activamente y ustedes lo saben lo saben porque es lo que ha pasado en el país vasco con la renta de garantía de ingresos

mientras cobraban la prestación de lanbide lo saben o quizás debería preguntarle por los votos que han conseguido con estas ayudas todos sabemos que se trata de una herramienta más de marketing

laboral y que en cambio da lugar a una sociedad subsidiada adormecida y perezosa que se jacta de vivir de las rentas no señores no

sánchez utilice a los españoles para pagar su hipoteca a los enemigos de españa se ha otorgado al país vasco la autonomía de gestión de ingreso mínimo vital de forma que

de segunda en el acceso a la renta según si viven en el país vasco o en el resto de las provincias de españa en situaciones excepcionales de crisis económica como la actual vox no está en contra de que los españoles más necesitados perciban una renta

para poder cubrir sus necesidades básicas pero no de forma permanente y a través de once programas nacionales de rentas mínimas y diecisiete autonómicos como en la actualidad el estado debe unificar y centralizar todas estas ayudas y garantizar el acceso por igual

ustedes mismos han podido comprobar los problemas que trae consigo las duplicidades y los ingresos indebidos como ustedes los llaman que ahora tienen que devolver muchos contribuyentes que han recibido ayudas por un lado del estado y por otro lado de lanbide el gobierno ha pasado muchos meses sin tomar medidas para proteger la economía

han atacado al turismo al comercio a la hostelería pero eso sí han cobrado la cuota de autónomos lo primero han empobrecido a los españoles y ahora se nos presentan como los grandes salvadores con la aprobación de esta renta mínima en vox se lo hemos dicho al comienzo no nos creemos al robin

por eso décimos que esto no es una película es la vida real y en el mundo real la gente quiere levantarse cada mañana e ir a abrir su negocio trabajar para sacar adelante a su familia y los trabajadores a su cargo esa no es nuestra meta

combatir la pobreza es un objetivo prioritario para vox y condenar a los españoles a vivir de la renta pública no es el camino para lograrlo muchas gracias

gracias presidenta buenos días de nuevo consejeros consejeras señorías bien sobre la cuestión de fondo ya todos nos hemos posicionado en los debates parlamentarios y en la cuestión en definitiva en relación con el ingreso mínimo vital y ese planteamiento y debate ya se llevó a cabo donde había que hacerlo

la cuestión de las transferencias claro y a la vista de la pnl que nos presentó

ya vimos que teníamos que votar que no en un planteamiento en contra de la pnl presentada por eh bildu claro que lo único que pretendía

una cuña una cuña política una cuña en el proceso de negociación de la transferencia que estaba abierto

de negociación y eh bildu pues aprovecharse también un poco de las inquietudes que manifestaba

de forma alguna vez de forma un poco exagerada y un poco descalificadora también

aprovechar un poco de esa bronca más o menos escenificada que había por ahí en relación con una cosa que estaba acordada y que tendría su proceso

les pueden y en ese sentido al pnv también le podían las prisas y lo escenificaba de una manera también a veces un poco

desconfiando y teniendo una visión un poco a veces dura en relación con algún proceso de negociación o alguna valoración que se hacía

hombre es que es una negociación la de la transferencia como todas pero cada una

que será complicada y que es complicada sobre todo por el importante carácter económico al que se refiere

de realizar reformas normativas para llevarla a cabo es una cuestión que no es baladí que tiene que hacerse y que tiene que asegurarse jurídicamente todas estas cosas se tienen que centrar y hay que hacerlo bien y cuanto antes cuanto antes no cuanto antes vale pero lo que hay que hacerlo primero es bien

cuestiones específicas de nuestra singularidad las cuestiones de respeto a la foralidad que también singulariza la cuestión en relación con ese proceso de negociación o sea que las cosas hay que hacerlas bien y por eso esa iniciativa inicial que presentaba la señora kortajarena quedaba totalmente desfasada yo en un momento ayer cuando

alguna declaración y tal he pensado bueno seguramente que retirará la iniciativa

por los planteamientos por algunas consideraciones que yo oí

por el ministro escrivá de seguridad social el otro día en el senado

pero bueno se nos presenta se transforma la iniciativa original en una enmienda pactada ahora

por todos los grupos del apoyo gubernamental del congreso de los diputados porque al fin y al cabo

esta iniciativa todos los grupos que son socios del gobierno

y del apoyo del congreso de los diputados y nosotros nos abstendremos no votaremos a favor a nosotros no nos parece correcta la expresión en este tema

de importancia jurídica cuanto antes nosotros entendemos que se hará

con todas las garantías legales y con todo el rigor económico y todo el rigor jurídico y presupuestario

en este caso el ministerio ha visto o ve algunos problemas

de proceder desde luego a la definitiva transparencia y habrá que tener esa voluntad de acuerdo y de

también el reconocimiento y la responsabilidad de hacer las cosas bien

y será en esas negociaciones cuando se ajusten todas las necesidades legales

que proceder cuanto antes o no sé pero bien pero por lo menos correctamente ajustándose al derecho y ajustándose

necesidades y al equilibrio económico del estado también o sea que en esas cuestiones está claro lo que hay que hacer y lo que nosotros entendemos como

y este proceso negociador está claro que lanbide tiene que

para gestionar con solvencia esta transferencia eso está así eso forma parte de los acuerdos y para ello necesita también cambios y

el proceder de lanbide tortuoso y suficiente en muchas ocasiones y ahora de repente se le presentan más retos

es una de las cuestiones primero que hay que analizar también y en ese sentido

con esa adecuación y esa modernización y esa mejora en la gestión

y esa gestión y trataremos de aportar a ese debate parece que cuando estamos hablando en este caso de la transferencia del ingreso mínimo vital

que se da y punto no la transferencia no ingreso mínimo vital pues no

por un trámite que es muy complejo y parece que estamos hablando más de esas cuestiones

para abordar las políticas que tenemos que gestionar pero no transferencia se da y punto hay que negociarlas y en ese caso nosotros mire nos gusta mucho el gobierno de españa pero sí que confiamos en este caso en que un ministerio que tiene que abordar en este caso el de la seguridad social un trámite como este lo haga con las mejores y las mayores garantías para el bien

sino para el bien de todos o sea que en ese sentido las transferencias son negociadas

de que la situación es gráfica pero desde luego para nosotros en el sentido absolutamente diferente de lo que decía la portavoz de eh bildu es decir porque ella hablaba de la matraca

se ve que a veces las transferencias y a veces esos procesos que forman parte de dinámicas vivas

o sea todo lo arregla la urgencia y si no es recentralizador ya hablaremos de recentralizador

la nueva ley de aportaciones ya hablaremos de la recentralización del gobierno vasco porque se le llena la boca

autonómicas vascas y sin embargo ahí están la erosión de las competencias hacia las diputaciones y los ayuntamientos por parte de lo que quieren aprobar en la ley de aportaciones

en el ministerio de seguridad social aborda el tema para que cualquier acuerdo al que se llegue sea justo y no desequilibre

mínimo vital en toda españa y eso desde luego es lo que hay que hacer que las administraciones acuerden las políticas en este caso las transferencias factibles y con rigor y a veces es difícil encajar todas las piezas y por eso hay que trabajarlo y en ese sentido pues en esa confianza estamos eso no quiere decir que independientemente de esa transferencia las administraciones la nuestra y todas las demás no estén trabajando en la cohesión social en la lucha contra la pobreza la exclusión

está bien claro que independientemente de la transferencia o no en este momento tenemos los instrumentos los mecanismos para que los más desfavorecidos vean mejorar su situación

pero vamos a hacerlo bien muchas gracias eskerrik asko

en el ministerio de la seguridad social ya eso es noticiable pero bueno y luego que usted no tiene prisa pues eso ya

y cuarenta y pico años después pues estamos como estamos no se trata de hacer como usted dice que las cosas se hagan bien ni de rigor

de falta de voluntad de los gobiernos de turno algunos de los cuales

euskadi y madrid desbloquean el ingreso mínimo vital beraz

eta amaitzeko eta eskualdatze hori era integralean emateko ze premiazkoa da y sí es sí es urgente no es que todo lo solucionemos con prisas sino que es urgente eta

izango dugu bai egia da el ingreso mínimo vital se nos presenta como una oportunidad

para que nuestro sistema que ya presenta unos síntomas de debilidad

espero que no vayamos a morir de éxito jada ibilbide luzeko sistema bat dugula

eco del optimismo del señor rico

tiene el convencimiento de que será así y de que desde luego la transferencia íntegra se

creemos que los compromisos alcanzados a diferentes niveles en fin

que el acuerdo se cumpla y creemos además que el pronunciamiento de los grupos parlamentarios que hoy han suscrito

y favorecerán que se haga desde luego cuanto antes porque efectivamente sí que creemos que cuanto antes debe ser cuando se haga la transferencia integral del ingreso mínimo vital y ya se le ha dicho al señor barrio

y de la técnica como excusa para dilatar los tiempos y más en cuestiones de este calibre creemos que también en ocasiones opera la voluntad política

y en lo que respecta a la voluntad política creemos que aquí se ha expresado una voluntad política muy concreta que es

y de manera urgente además creemos que será así porque ni siquiera su grupo parlamentario entiendo plantea lo contrario es decir más allá del tiempo y del rigor y de las garantías en el proceso considera que

a que en este sentido se sume a ese pronunciamiento y que pase de la abstención al sí en cualquier caso nos parece

y también la existencia de sectores sociales cronificados en la pobreza sí se ha dicho por parte del portavoz del pnv y que desde luego el sistema de prestaciones sociales vasco

a esto que opera hoy en día y que es una lacra para nuestra sociedad sí que no he entendido muy bien la referencia a que en cuanto a la contención de la pobreza

por qué un sistema de prestaciones sociales iba a condicionar la generación de riqueza de una sociedad si me lo explica se lo agradecería

y desde luego toda nuestra voluntad como grupo parlamentario en

y en este sentido le contesto al señor rico responsabilidad y altura de miras sí desde luego

y en el trámite que corresponda lo haremos con las discrepancias

posiciones porque creemos que será para el bien de la ciudadanía y si

esa voluntad también es recíproca seguramente que alcanzaremos acuerdos eskerrik asko eskerrik asko soto jauna euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

en que se proceda a la transferencia y además en que esa transferencia se integre dentro de nuestro sistema de garantía de ingresos y eso es lo que hemos defendido siempre los socialistas

no hay plan b y como no es una pose es lo que trasladamos desde el primer momento al gobierno de españa y es verdad que esa transferencia se está haciendo de rogar sí

con una voluntad bastante contrastada de diálogo y de intención y en este sentido es en el que hemos trabajado y seguiremos trabajando por lograr la transferencia

de garantía de ingresos y fíjense tanto creemos en eso y estamos tan convencidos

redactado por el departamento de trabajo y empleo se contempla esta realidad del ingreso mínimo vital quería hacer dos apuntes algunas

de la seguridad social porque sí el ingreso mínimo vital depende del ministerio que lleva ese nombre pero lleva también el nombre de migraciones inclusión inclusión repito

porque si nos vamos al presupuesto no tiene nada que ver con el presupuesto de la seguridad social sino que va contra los presupuestos generales por eso yo creo que no es más que extemporáneo sacar determinados debates y unirlos porque cada cosa tendrá su tiempo y como sabemos

que no debe ser mezclado en alguna de las cuestiones

el señor soto mi grupo está abierto a todos los debates pero cuando hacemos una mejora estructural creemos que es importante aplicar un principio

algunas de las cuestiones que se recogen en su enmienda que usted ha comentado también

son viejos debates que se han dado en este parlamento

avanzadas las rentas también son condicionadas muy condicionadas países que concebimos como modélicos que hasta lo condicionan a diez años de residencia legal y efectiva por ejemplo pero es que entre esas rentas condicionadas

es que entre las rentas condicionadas también está el ingreso mínimo vital el proyecto que se ha elaborado por parte del departamento está comprometido con el programa de gobierno y recoge ese modelo

más ágil y más fácil para los perceptores y para los trabajadores que les he hablado

adonde hay mayores y por cierto toma como referencia la cuantía base precisamente

y a partir de ahí se articulan los complementos y no va a ser el grupo socialista el que entrae en comparaciones porque pensamos que lo que ha hecho el gobierno de pedro sánchez ha sido valiente y además se ha fijado en nuestro sistema pero si todos ustedes han mirado la ley verán que la ley complementa mejor

y además porque se recogen muchas mejoras de las que se aportaron en la pasada legislatura

que se hizo también por parte sus grupos en la pasada legislatura no lo desprecien porque es legítimo tener otro modelo y eso es así es legítimo

y en su contrario quien tiene razones de orgullo para el ingreso mínimo vital tiene más razones de orgullo

la diferencia no puede ser si estamos en un gobierno o en otro entonces a eso nos vamos a emplazar y yo creo que entre todos podremos conseguir ese objetivo que como les he dicho antes comparto que es común nada más gracias

gracias señora presidenta quiero en primer lugar mandar desde aquí un cariñoso recuerdo y abrazo

la isla canaria tan afectada por la erupción volcánica hoy

para que cada centro educativo pueda elegir si prefiere

o continua esto es exactamente el objeto de nuestra

por tanto antes de nada debo decir que no voy a defender aquí a ultranza la jornada continua ni voy a presentarla como una panacea frente a la jornada partida

ya muy probadas en todos los sitios tienen detractores y defensores pero como ustedes saben

y por lo tanto preferimos que sea cada centro educativo el que elija el tipo de jornada que prefiere y en eso consiste nuestra propuesta no es por tanto una iniciativa contra la jornada partida sino a favor

y creemos que se hace necesaria porque la situación actual en euskadi es que no hay opción de elegir

por decreto por el departamento de educación a todos los centros educativos sin más matices sin más consideraciones sin estudios de ningún tipo

ni la opinión de los docentes en el curso anterior se hizo una excepción como todos saben por la pandemia y de hecho

pero otra vez hemos vuelto a las andadas a la imposición de la jornada continua para

en noviembre del año pasado compareció en la comisión de educación la a favor de la jornada continua en euskadi que recoge el sentir de miles de padres y de profesores en un movimiento

en el resto de españa y en europa para evitar malos entendidos

a qué me refiero cuando hablamos de jornada continua porque he percibido que en ocasiones se entienden

y se le dan significados que no son a lo que nos estamos queriendo referir desde nuestro punto de vista la jornada continua no es más que una reorganización del horario escolar de forma que las cinco horas lectivas se agrupen en un horario de nueve a dos en un horario de mañana y situemos el horario de comedor después de las mismas permitiendo así que al terminar las clases los padres que lo prefieran puedan

puedan dejarlo en el colegio haciendo uso del comedor escolar

de forma que no se cambie la hora de salida es decir se trata de ampliar opciones se trata de que cada uno elija cuántas horas y cómo quiere que esté el niño en el colegio

que lo veía así sino solo de dar la opción de que los niños puedan comer en casa sin necesidad de hacer cuatro paseo diarios y que las familias que no puedan o no quieran elegir esta opción no pasa nada no les cambia nada

las mismas horas exactamente y no hay ningún problema de conciliación pero como ya hemos dicho aceptamos que hay argumentos a favor y en contra de los dos modelos y es por eso que lo que defendemos realmente es la libertad de elección es decir que cada centro se organice

hay que tener en cuenta otros muchos aspectos como las repercusiones económicas de los comedores los intereses políticos los derechos laborales de los profesores la conciliación de la familias etcétera porque desde el punto de vista psicopedagógico

que los hay en un sentido y en otro pero sí les puedo resumir diciendo que los

no encuentran evidencias científicas relevantes a favor de ninguno de los dos modelos luego parece que el tema no es muy

sí que parece que avanza la conclusión de que los niños rinden más

pero es que esto es de sentido común nos pasa a todos por la mañana rendimos más las clases de la tarde nos cuesta más a los alumnos y a los profesores y yo he dado clase muchas veces por la tarde y entiendo que son más pesadas para todos es lógico que todos estemos más cansados por la tarde que por la mañana

que comunidades autónomas con tasas muy altas de centros con jornada continua

pero me parece poco riguroso concluir que sea debido al modelo de jornada seguramente que están influyendo otros muchos factores pero ahí está el dato la libertad de elección no supone generar inconvenientes a nadie

pueden seguir manteniendo al niño en el colegio hasta la misma hora que antes

se le genere ningún tipo de problema ni de conciliación ni nada por el estilo porque después de comer se pueden realizar actividades extraescolares hasta completar el horario y entonces alguno se preguntará y entonces dónde está la diferencia bueno pues en algo importante en que cada familia puede decidir

y ahora no pueden decidirlo esa es la diferencia fundamental y hay muchas familias que pueden y les gustaría comer con los niños que prefieren darles otro tipo de alimentación más casera

o que simplemente no quieren gastar más dinero en el comedor escolar hay familias hay muchas familias que les pasa esto

para los profesores su horario no cambiaría pero sí que tendrían sus horas docente centradas por la mañana

a hacer reuniones o a la planificación y preparación docente y subrayo lo de la formación porque es un tema que me preocupa mucho y creo que es muy importante y que tendremos que atender especialmente a su propia formación creo que es importante que los profesores dediquen más tiempo del que dedican a su propia formación

hay que tener en cuenta que en la mayor parte de las familias trabajan los dos padres y que muy poco de ellos pueden permitirse ir a buscar al niño al colegio a la una volver a llevarlo a las tres

especialmente son las familias más desfavorecidas las que no pueden dejar de trabajar para hacer los cuatro paseos diarios con lo que se ven abocados

en el comedor escolar y a tener que pagar por cierto los casi cien euros mensuales por cada uno de los hijos que les cuesta

por tanto creemos que son las familias desfavorecidas justamente las más beneficiadas con la capacidad de elección

con el horario del colegio simplemente es ampliar opciones dar a la gente a elegir que cada uno pueda adaptarse según

que con la jornada partida en invierno en euskadi los niños salen casi de noche del colegio y les queda muy poco tiempo muy poca capacidad para jugar al aire libre

es decir les estamos imponiendo un horario que no respeta sus tiempos de descanso ni sus tiempos de ocio entendemos

por el contrario que no pueden atender a los niños a las dos de la tarde por motivos laborales la mayoría pero repito no hay problema porque nuestra propuesta contempla la posibilidad de que los padres que lo deseen o lo necesiten

por otro lado a veces se dice que no dejar a los niños a comer en el colegio es quitar la única comida variada que muchas familias pueden ofrecer a sus hijos en este tema hemos visto que hay una corriente importante de defensa de los comedores escolares

por encima de la defensa de los intereses de los niños la respuesta es la misma eh el que quiera

pero será opcional no tendrán que dejarlo necesariamente

uno de los problemas principales que es la defensa de todo el negocio que hay detrás de los comedores escolares y en fin no podemos evitar acordarnos del escándalo de las empresas de catering que sí es cierto que perderían facturación recordemos que en euskadi entre dos mil tres y dos mil quince las empresas de catering pactaron el precio de los menús y se repartieron el mercado de los comedores escolares produciendo un sobrecoste a los usuarios que se calculó en setenta millónes de euros fue el llamado cártel de los comedores que acabó con una sentencia del tribunal superior de justicia del país vasco obligando a pagar a las ocho empresas

es decir los comedores escolares además de otras cosas son un gran negocio y no entendemos qué se hace o qué hacen ciertos partidos defendiendo los intereses privados de esas empresas

y no entendemos que se hace presionando activamente para evitar que se desmonte este negocio aunque sea forzando a las familias a aceptar un gasto mensual muy relevante que incrementa

el euskera los defensores del euskera obligatorio han manifestado su preocupación en diferentes ocasiones en este pleno y en las comisiones porque en el periodo reciente en la pandemia cuando se ha reducido el tiempo de presencialidad en el centro se ha reducido también los niveles de uso del euskera es decir cuando a los alumnos les dejan elegir la lengua

baja el nivel de uso del euskera y claro es cierto si hay alumnos que deciden salir a las dos del centro muchos de ellos se ven liberados del uso del euskera obligatorio y esto no nos parece aceptable porque mejor que nadie pueda elegir y que tengan que hablar euskera quieran o no verdad y cómo está este asunto en otros lugares

la única comunidad autónoma en españa que aún no permite este mecanismo de elección por tanto estamos en la cola en esta materia que supondría un cierto avance democrático

en eso bachillerato y universidad está implantada en prácticamente todos los centros públicos y concertados en galicia en mil novecientos ochenta y ocho se publicó la normativa para el cambio de jornada y a día de hoy todos los centros públicos tienen jornada continua le siguieron canarias andalucía castilla y león castilla la mancha extremadura murcia madrid

solo falta euskadi y cataluña casualmente las dos comunidades gobernadas por el nacionalismo casualmente

establecen diferentes requisitos en el caso de aragón por ejemplo el setenta por ciento de las familias

y además los centros deben contemplar actividades complementarias gratuitas

pero tenemos un dato interesante y es que ningún colegio que ha aprobado la jornada continua

en europa tenemos el caso de alemania donde la jornada continua está implantada de manera generalizada por eso nuestra propuesta es muy clara

decida libremente el tipo de jornada escolar en la educación infantil y primaria proponemos también que en aquellos centros que se instaure el modelo de jornada continua se garantice la permanencia del alumnado que así lo desee

así como garantizar el servicio de comedor escolar y transporte y proponemos también

para conocer el grado de satisfacción del alumnado familias y docentes respecto al modelo de jornada elegido por cada centro este es el verdadero estudio que hay que hacer el que se implante y se vea si funciona o no y que pasa más allá de que ya está aprobadísimo en otros muchos sitios pero por último también proponemos que se elabore a la mayor brevedad posible un plan de veinticinco centros piloto para empezar por ejemplo

no hace falta hacerlo para todos se puede empezar por un grupo pequeño de colegios y ver qué pasa se trata por tanto de dar un paso más en la defensa de la autonomía de los centros educativos se trata de dar opciones a las familias para que puedan conciliar mejor y se trata

horri erantzun behar ez badiote lo decíamos es cierto

tienen grandes dificultades para conciliar la vida escolar laboral y familiar y es cierto que para corregir esas rupturas y armonizar los horarios y garantizar modelos de cuidados es imprescindible pues eso amortizar los horarios de acuerdo pero lo que no puede ser es que pongamos sobre el sistema educativo la responsabilidad entera de la conciliación

no le corresponde responder a este reto de forma unilateral menos aun votando en cada centro

esto no es serio no es serio no perdamos nunca de vista

y educativo del alumnado etapa por etapa son las necesidades educativas las que tienen que estar en la base y en el centro de las jornadas y nada más si no van a responder en primer lugar a esto

y a todo lo demás corresponde directamente a las políticas públicas de conciliación

hablamos de autonomía y de derecho a decidir proyectos educativos diseñados y desarrollados por las propias comunidades

en cada centro de forma comunitaria y en colaboración con los agentes de su entorno desde lo local respetando las necesidades educativas del alumnado en cada etapa y en base todo ello a la jornada pero no podemos empezar la casa por el tejado

no la jornada tiene que responder a un proyecto educativo y no al revés primero proyecto

nunca son nuestros nunca nos vienen dados suceden y tenemos que aprender a conquistarlos esto es una adaptación del manifiesto por una educación sin muros

a llamarlo el manifiesto por una educación sin tiempos hoy debatimos a propuesta del grupo popular ciudadanos sobre la autonomía de los centros para que puedan decidir

y si hablamos de tiempo no hablamos solo de horario y no hablamos solo de jornada por ello

desde un punto de partida integral y desde el indiscutible parámetro de poner el interés superior del alumno o de la alumna y vincularlo al proyecto educativo y pedagógico del centro

desde la que parte de mi grupo parlamentario elkarrekin podemos izquierda unida ahora

no debemos apurarnos haciendo consultas vinculantes actuaciones inmediatas proyectos piloto sin una valoración previa y bien informada y mucho menos claudicar ante intereses o presiones parciales eskola eguneko eztabaida

eta gizartean eta horretarako datuak behar ditugu cuando hablamos de tiempo escolar hablamos de un proyecto pedagógico y no hay cambio que valga si no se sustenta en un acuerdo social que vaya más allá del estrictamente educativo que huya de actuaciones puntuales que se base educativa y social priorizando lo público que potencie el consenso y la acción colectiva que sea suficientemente flexible para dar respuesta a la diversidad social en el que la administración además asuma la gobernabilidad del tiempo educativo

evidencias y evaluación sistemática los modelos tanto en el resto del estado como en otros países de la unión europea constatan que estas

egiten dutela organismos internacionales como la unesco señalan que la educación integral de la infancia está asociada directamente a los tiempos escolares pero también a otros del ámbito social y familiar y todos

por ello como está ocurriendo en otros países y otras comunidades este debate debería plantearse como un debate abierto y responsable y tratar de acomodar de la forma científica más científica posible los tiempos educativos a la dinámica social a los nuevos paradigmas educativos y la mejora del rendimiento del alumno

asegurar que la comunidad educativa decida que la jornada sea un recurso para la mejora del desarrollo integral y el rendimiento de todo el alumnado bigarren puntua el de cohesión social no

o que no tienen recursos económicos para pagar actividades extraescolares fuera del centro ikasle guztiek dute kalitatezko eskolaz kanpoko jardueratik ikasteko

desde la calidad pedagógica asegurar que la organización escolar de los tiempos escolares esté basada en criterios de innovación y en el conocimiento que nos ofrecen

y se titula a las tres en casa el impacto social y educativo de la jornada escolar

dice que las evidencias demuestran que compactar la jornada acentúa algunas

que ya existen y que es particularmente lesiva para algunos sectores sociales dice también que hay que replantear la jornada escolar en beneficio de niños y niñas y jóvenes con nuevas formas de organización del tiempo en la escuela y en la sociedad replantearlo significa distinguir

y el horario de la actividad educativa buscando además nuevas fórmulas que satisfagan los intereses laborales

dice también el estudio que se debe trabajar en proyectos de integración del tiempo lectivo y no lectivo construyendo redes que incluyan a las administraciones locales

socioeducativos del entorno y las familias y por último dice que la autonomía del centro es fundamental pero que no debe estar reñida con buscar cierto equilibrio

de oportunidades educativas todos los estudios que se han hecho en otros territorios parecen indicar que la solución a los problemas

familiares y laborales no pasa solo por modificar los horarios de niños niñas y adolescentes unilateralmente sino que otra pieza clave de este puzle que encima les encaja el rompecabezas

y con todo esto lo que proponemos desde elkarrekin podemos izquierda unida es que se estudie que se investigue sobre la incidencia de los horarios pero en un sentido amplio con enfoque de género y considerando el impacto que estos horarios tienen sobre

en materia de conciliación y corresponsabilidad en el uso de los comedores escolares y sobre todo en el impacto que tiene en la infancia y en las familias

unas palabras del experto gonzález larrucea que decía que mucho se ha debatido y mucho falta por debatir en euskadi

pero que ese debate no se ha dado en nuestra comunidad sino que se va dando por la vía de los hechos consumados eta uste dut euzko abertzaleak eta

eskerrik asko arrizabalaga andrea señor gil no creemos que la iniciativa que presentan

sí creemos en el derecho a decidir de cada centro pero estas decisiones requieren de avales cuantitativos

puede estar escorada hacia clases privilegiadas o con intereses muy concretos

hace prevalecer su decisión sobre una minoría vulnerable no obstante hay algunos aspectos de su iniciativa que sí que me resultan interesantes

como por ejemplo el tema de garantizar el comedor y el transporte o la evaluación periódica

buenos días hoy nos toca debatir una propuesta presentada inicialmente por el grupo popular ciudadanos para defender la implantación de la jornada continua en las aulas

y he decirle señor gil que me da la impresión y ahí coincido con la señora garde y la señora gonzález que es quizás excesivamente reduccionista limitar todo el problema que se dé

a si se establece o no la posibilidad de optar o no por la jornada continua

hay muchos más aspectos que tienen que operar a la hora de tomar decisiones en ese sentido por eso hemos defendido y quiero

el que se haga un estudio serio antes de tomar cualquier decisión porque

en la que una determinada parte de los centros escolares se puedan sentir o de las familias de esos centros ninguneadas respecto a sus verdaderos problemas hay muchos más problemas que la jornada partida por desgracia en las aulas de los colegios vascos

hace ya unos meses en la comisión de educación fundamentalmente en aquel momento los motivos se basaban en criterios de conciliación

teniendo en cuenta la situación de pandemia que ya vivíamos en esos momentos y es verdad que actualmente son varias las comunidades autónomas que han autorizado de una u otra manera

aunque con distintas características entre ellas por otro lado euskadi y cataluña son dos comunidades que se han opuesto

por motivos fundamentalmente pedagógicos explican basándose en la opinión de personas expertas porque como bien decía el señor gil hay opiniones contradictorias

y por considerar que este horario facilita la igualdad de oportunidades entre el alumnado el actual me refiero además de una mayor equidad también se ha tenido en cuenta la necesidad de conciliación

da más opciones a las familias con más problemas las más vulnerables entendiendo que las familias con más recursos pueden dar más opciones a sus hijos e hijas a las tardes

o simplemente tienen problemas laborales por falta de empleo la escuela en este sentido opera como un punto de equidad y entendemos

es un sistema más justo en el caso de la

ya está implantada en prácticamente todos los centros públicos y concertados y en prácticamente todas las comunidades autónomas en los centros de educación infantil y primaria es donde hay más diferencias

en las que la jornada intensiva no se ha conseguido hasta la fecha abrir paso la realidad del problema que se planteó durante la pandemia

afortunadamente lo peor de la pandemia en todo caso actualmente la normativa interna de educación en el caso vasco impediría actualmente la aplicación

los socialistas respetamos este criterio pero como es conocido es verdad que la postura del partido socialista

es favorable a la posible aplicación de dicha jornada continua previo debate en cada centro en el seno de la comunidad educativa en la que ahí le doy la razón a la señora garde hay que hablar de más cosas que simplemente si hay jornada partida

por tanto lo que viene a recoger nuestra enmienda es en resumen mantener la situación actual pero abriendo un período de reflexión diagnóstico o estudio serio

siempre y cuando en cualquier caso exista una mayoría muy clara en el seno de la comunidad escolar entendemos las razones que desde el punto de vista de conciliación de las familias al menos de algunas de ellas puedan justificar dicha petición pero desde luego entendemos también las razones de carácter pedagógico que plantea el departamento

o jornada partida en los colegios parece a veces una cuestión

sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora no ha habido ningún estudio concluyente que apueste de manera tajante por ninguno de los dos modelos por motivos pedagógicos y por eso hay diversidad de opiniones y los que desde luego señor gil mantenemos dudas sobre la conveniencia o no de esta jornada

ninguna de las dos cosas en resumen aunque los colegios cumplen una función básica de conciliación entre la vida laboral y familiar padres y madres es cierto también es cierto que las escuelas no están pensadas para eso ni esa es su función principal

poner a los colegios en el centro del debate de la conciliación pone de manifiesto por desgracia que faltan todavía muchas políticas reales de conciliación

en los centros educativos un debate al respecto y que una vez analizadas todas sus vertientes estas pueden estudiarse por el departamento de educación previo

que es lo que hemos pactado con la señora gonzález representante de podemos un estudio serio que establezca los pros y los contras de esa situación

no compartimos la propuesta que presentan ustedes en la enmienda de que se establezca ya una experiencia piloto sin estudio previo de ninguna clase la jornada continua en los centros que lo hayan solicitado debe seguir continuando

pero lo que sí creemos y en eso sí estamos de acuerdo con usted es en que hay que abrir ese debate pero no solo el debate sobre si hay jornada partida

sobre los centros públicos y el sistema educativo vasco que espero que la ocasión que nos brinda la puesta en marcha de la nueva ley de educación sirva también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

como decía más allá de titulares que a primeras nos pueden sonar muy atractivos a mí también

entendemos que son más y de más peso los argumentos en favor

previo sin rigor sin saber qué efectos pudiera tener

esta permite al alumnado organizarse mejor para estudiar y hacer otras actividades y esto realmente así puede sonar

pero también se ha llegado a asegurar y hoy aquí lo ha hecho el señor gil

por ejemplo entre otras cosas para que las empresas de catering no ganen menos y este debate se merece profundizar

menos y espero tener oportunidad de profundizar en el tema de los comedores más adelante si tengo tiempo en mayo de dos mil veintiuno se hacía pública una encuesta en la que

entre las que se incluían progenitores alumnos y alumnas y docentes y que indicaba que el noventa y cuatro coma siete

continua en las escuelas vascas vuelvo a repetir

eso es mucho eso es poco kontuan hartu behar dugu aurtengo ikasturte honetan ikasleak bakarrik

bildarratz explicada hablando de la jornada

es el alumnado que hay estudios y que se ha hablado con especialistas que se ha analizado el tema y que aconsejan

y que además entiende el departamento que la escuela juega también un papel de equidad que quiere decir que fuera del centro aquellos que tienen más problemas fuera del centro los alumnos las alumnas que más sufren y que menos recursos tienen

de un mayor equilibrio y que se entiende que la jornada partida dota de mayores recursos y

en general que habrá excepciones pero que en general es así y también decía el consejero

y que las especialistas dicen que un elemento importante es que la jornada

y que lo contrario no haría más que generar controversia y división entre las familias por tanto señor gil el análisis pedagógico es indispensable

el centro el objetivo de hauspoa es la flexibilización del marco actualmente vigente para facilitar la organización de actividades educativas y de los tiempos escolares del centro en aras de mejorar la calidad de la enseñanza para fomentar el éxito educativo de todo

y el comedor escolar debe ser una herramienta educativa complementaria que lo es que tiene unos objetivos muy importantes pero que convertirlo en opcional

porque puede tener muchísimas consecuencias negativas para un colectivo

en este caso y lo hemos visto además que ha ocurrido en pandemia

he escuchado con mucha atención tenía mucho interés en conocer cuáles eran los argumentos que cada uno de los grupos iba a exponer

la verdad que me he quedado un poco defraudado no he encontrado argumentos en contra de que los centros puedan decidir lo digo porque señor pastor que no que no he defendido aquí la jornada partida ni la jornada continua que no es eso es que

estaba defendiendo la libertad para que cada centro elija lo que considere oportuno

cosa que me alegra mucho la primera de ellas estamos todos de acuerdo entiendo

y que sean los intereses del niño los que inspiren cualquier modificación

estamos también todos de acuerdo en defender y me ha alegrado mucho esto la autonomía de los centros pero claro en ese tema ya parece que no autonomía de los centros sí pero para esto no

estamos de acuerdo también en que este tema debería de no suponer ningún problema para las familias que decidan

apostar por la jornada continua bien dicho eso observo que

llamando populista a la propuesta y cosas por el estilo porque creo que no aportan nada y no son positivas sí que me parece que cuando estamos hablando de la autonomía del centro

de acuerdo si el centro debe de tener autonomía para votar su proyecto educativo yo no digo que eso se vote separadamente metamos esto dentro del proyecto educativo

pueda decidir si utiliza una jornada u otra dentro de su proyecto educativo esto hoy no es posible hoy la jornada partida es obligatoria repito por tanto aquí con la situación actual lo que se está defendiendo no hay autonomía de centros real sobre este aspecto eh sobre otros lo discutiremos otro día que la cosa es más compleja señora gonzález

hemos hablado de jornadas continuas distintas por eso al principio de mi intervención me he esforzado por explicar lo que yo quería decir con jornada continua pero en la jornada continua que nosotros planteamos no es verdad que esto privilegie a ninguna clase privilegiada al revés

adapte este tema a sus propias necesidades y bueno

y es verdad que hay que estudiarlos todos pero ahora estamos en concreto con este tema señor pastor no estamos hablando de otros digo es que decir que no a esto porque hay otros muchos problemas en los centros educativos ya y qué sí claro que hay muchos problemas y hay que solucionarlos claro hablamos de que

decía el señor pastor sí sí claro y si no también porque ahora mismo también hay familias ninguneadas familias que querrían una jornada continua

que no les hacemos ni caso que sus necesidades no cuentan para nada

la jornada continua pues coherencia señor pastor y que ustedes consideran que se debe abrir un debate al respecto bueno bien

si creen que hay que hacer más estudios como han defendido etcétera bueno primero

pero claro como es españa igual no nos interesa mirar lo que pasa allí es igual aquí también hemos tenido en la época de la pandemia muchos centros con jornada continua si podemos ver lo que ha pasado y podemos han sido las consecuencias y hemos visto y podemos preguntar también a la gente cómo lo ha visto pero señora

lo que no he querido es meterme en los tecnicismos de qué opinan unos expertos y que opinan otros porque efectivamente

lo que sí creemos es que el debate psicopedagógico no es concluyente es decir que no hay conclusiones muy claras

en fin en todo caso creo que lo que estamos haciendo es dar una patada al balón para adelante con el fin de no decidir con el fin de mantener la postura que ya teníamos y esto muestra efectivamente una cierta incapacidad

creo que necesitamos una gestión mucho más flexible mucho más dinámica mucho más adaptada a las demandas de la sociedad sin más muchas gracias eskerrik asko

cuando ha empezado su intervención esta mañana diciendo soy liberal

pero bueno al decirlo así es como aquí estoy quería comentarle algunas de las cosas que ha dicho antes en su intervención

bueno yo creo que es muchísimo más que una reorganización del horario y coincido con usted que además tiene dijo usted tiene cierta complejidad tiene muchísima complejidad

de datos y de aspectos que hay que contemplar que dicen que es complejísimo también comentaba que había estudios a favor y en contra hay muchísimos incluso algunos falsos porque cuanto más profundiza una en un tema acaba encontrando

pero en este caso en investigaciones sobre el tema de la jornada intensiva o de la jornada partida y casi todas además vienen condicionadas

y que son encima muchos lobbies privilegiados cuando hablábamos de clases privilegiadas y de grupos privilegiados es verdad que a veces hay unas minorías privilegiadas

tapan a las minorías vulnerables hablaba también de la defensa de los comedores escolares por encima de la defensa de los niños yo eso bueno no he entendido muy bien esa parte

han sido y son un negocio y eso todas lo sabemos y lo hemos vivido pero además consideramos que es un servicio fundamental nosotras apostamos por que los comedores escolares el tiempo del comedor escolar sea un tiempo educativo

y aparte que lo que se consuma en el comedor escolar lo sea también

es que vivimos en una comunidad en la que tenemos dos lenguas oficiales dos lenguas oficiales la escuela la escuela y especialmente la escuela pública

se sienten pertenecientes a la comunidad donde viven

y el tiempo escolar es un tiempo valiosísimo para la inmersión lingüística y

respecto a lo que comentaba la señora garde

yo coincido coincido con usted es que es una pena que no se hiciese

y en este caso apelo desde aquí también al gobierno que tenía la obligación de hacer ese estudio y que no se hizo y que este estudio que hemos acordado hoy

sobre la mesa comentaba el señor pastor sobre la futura ley de educación bueno como hay tanto ruido vamos a dejarlo pasar

esa futura ley de educación tiene algo que ver con todo lo que planteamos aquí los grupos respecto al horario escolar y a los horarios de la vida y de la conciliación y a los horarios de las personas

y de las niñas y de los niños voy a acabar como empecé con el manifiesto

sin barreras aprendemos de la vida la educación es un tiempo y un lugar para la negociación es una puerta entreabierta pero también es un reloj que no marca las horas que permite escapar de la endogamia del sistema

menos transitado los espacios los tiempos de enseñanza y aprendizaje nunca nunca son nuestros nos vienen dados

que defendemos la autonomía de los centros señor gil garde

y si han seguido muchos de los debates que se han desarrollado en este último año pues me habrán oído repetirlo una y otra vez y también al consejero

pero ustedes proponían cosas muy muy

sin tener ni idea de qué efectos pudieran traer porque como usted mismo ha dicho

entonces como comprenderá un punto formulado de ese modo

sin un abordaje estructurado y sin tener en cuenta vuelvo a repetir las necesidades del alumnado y las consecuencias que pudiera tener una decisión de este tipo

no nos parece cuanto menos responsable entonces hablamos de qué es lo que va primero el estudio

nosotros creemos que primero tiene que ir el estudio porque eso sí que es riguroso y eso sí que es responsable y esto es poner el alumnado en el centro no creen ustedes que tiene más sentido esto que le acabo

y después apostar o al menos que los centros tengan la oportunidad de apostar

en materia de conciliación y corresponsabilidad con un enfoque de género y en el uso de los comedores escolares el posible impacto en las familias en situación de vulnerabilidad

no creen que es mejor que los centros dentro de esa autonomía de su autonomía

más adecuada basándose en lo que concluya ese estudio y encima nos habla de excepcionalidades hablaba de la excepcionalidad de euskadi y de cataluña

tiene esa excepcionalidad por ejemplo en cuanto al sistema de redes concertación red pública red concertada y a ustedes ese tema nunca les ha molestado

un problema porque cada comunidad tiene las especificidades que tiene

y por eso actuamos de este modo siempre atendiendo con responsabilidad no tendría sentido ningún sentido y esto también

sin tener las conclusiones solamente porque los centros tienen esa potestad

al alumno en el centro trabajar evaluar y analizar las consecuencias de las actuaciones en función de las necesidades del alumnado y no en base a la autonomía per sé de los centros que la tienen por supuesto pero habrá que pensar primero en qué afecciones puede tener beraz zuen zuzenketak

jartzeko caminamos hacia la ansiada normalidad y los datos

lo atestiguan pero sin duda también todos somos conscientes de que vamos a un escenario de convivencia con el virus y sí que consideramos que en ese escenario obviamente sigue siendo necesaria avanzar en la vacunación llegar al noventa y nueve al noventa por ciento de la población vacunada que disminuya la presión hospitalaria

de contagios sin duda también en el escenario que camina hacia la normalidad pueden existir algunas incertidumbres pero que todos esperamos y los expertos y los científicos que trabajan en estos temas

esperanzador en el sentido de que bueno pues no tengan la virulencia

de las anteriores sobre todo porque la mayoría de la población pueda estar

sí que es cierto que ayer se notificaron ciento treinta casos tenemos que decir que sí en el ranking de los contagios a nivel nacional seguimos en el top

con las personas más contagiadas comparativamente con el resto de comunidades autónomas aunque vaya bajando esa cifra y la tabla de incidencia acumulada ayer también a catorce días se situó en ciento nueve en ehun eta bederatzi

y sí que consideramos que es un número obviamente que sigue siendo excesivo y obviamente hay que lamentar cualquier víctima que haya en relación

a este virus y a esta pandemia y las personas que están ingresadas en

ayer en la cifra también que hemos conocido eran en este momento son cuarenta y nueve momentu honetan pentsatzen dugu garrantzitsua dela

hacer frente a los brotes de las enfermedades infecciosas emergentes hacer reformas en las estructuras sanitarias de osakidetza

de los existentes de expertos científicos pero sí que es cierto que no consideramos necesario una comisión de estudio porque entendemos que hay herramientas suficientes que hay muchas de las cuestiones que ya se han detectadas en las que hay un margen

sentido hay un trabajo ya realizado que podemos avanzar

considerando que hay margen de mejora en ese sentido desde el grupo popular vasco en nuestra enmienda hemos recogido algunos de los puntos en los que consideramos que hay que incidir y que son fundamentales para

futuro pues poder prevenir este tipo de situaciones de pandemias de enfermedades infecciosas y sobre todo como decía contando con las herramientas que ya tenemos a nuestra disposición y que muchas de ellas consideramos que pueden ser reforzadas o que

debidamente en la gestión de esta pandemia en ese sentido proponemos reforzar las unidades de vigilancia epidemiológica y el servicio de epidemiología de la dirección de salud pública

y difunda los informes que aglutinen toda la información relativa a esta pandemia como ha hecho referencia la proponente existe un informe

culminado pueda ser revisado pueda ser actualizado consideramos que ya es una herramienta

al futuro y a situaciones semejantes por otra parte consideramos importante adoptar

que garanticen en los espacios cerrados la suficiente frecuencia de la renovación del aire esto es un punto

a través de nuestras propuestas a través de una enmienda a la ley anti pandemia en euskadi sobre todo teniendo en cuenta

más estrecha se va a interactuar como decía en este tipo de espacios que sin duda

ventilación o renovación del aire por otra parte también instamos al gobierno vasco a algo que creo que lo planteamos de forma sistemática porque creemos que es donde hay que hacer también hincapié y sin duda es un aspecto a reforzar que ha quedado de manifiesto en el que hay deficiencias como es el ámbito de la atención primaria

sanitario y en este sentido proponemos revisar la estrategia que ya fuimos críticos en su momento la estrategia elaborada ya en las legislaturas anteriores

como humanos que en este momento necesita la atención primaria y en donde puede haber un déficit de los

a la ausencia o al déficit de profesionales en este ámbito y por otra parte y dado que también una de las cuestiones

las situaciones de covid persistente esta patología que obviamente hay que trabajar en ella hay que atender a estos enfermos

y en ese sentido también consideramos importante incorporar en los diferentes planes de formación información actualizada sobre esta patología y reforzar

denoi nuestra coalición no ha presentado ninguna enmienda a la iniciativa que nos propone

la señora ubera creemos que es una enmienda que propone una cosa

de esa comisión parlamentaria a la que ha hecho referencia

para oponernos a la creación de esa comisión pensamos que es un posible espacio democrático parlamentario de análisis de debate de una cuestión que efectivamente es una cuestión de salud pública pero es una cuestión de salud pública muy concreta

con las posibles futuras pandemias y es una cuestión de salud pública pero es una cuestión de salud pública concreta y por lo tanto

para oponernos y por lo tanto no hemos hecho ningún tipo de enmienda

votaremos a favor pensamos que es una posibilidad crear esa comisión

de nuestra enmienda y de nuestra posición en la votación pensamos que ese tipo de comisión no genera ningún tipo de disfunciones a la acción del gobierno y menos a la acción del gobierno en estos momentos con la pandemia covid porque además

no se pretende hablar de la covid aunque lógicamente la experiencia de esta pandemia covid

al gobierno y a la acción del gobierno en estos momentos voy a referirme también a la enmienda del partido popular de la señora garrido entre otras cosas porque aunque a mí me cueste decir esta frase

prácticamente absolutamente de acuerdo con la enmienda que presenta el partido popular

ya tuve la ocasión de decir en este parlamento que nuestra coalición se posiciona aquí respecto al resto de grupos en base a los contenidos concretos muchas de las cosas que ha planteado la señora garrido

las hemos venido planteando y creemos que es acertado tal vez no todas y tal vez a nosotros nos hubiera gustado en ese caso si hubiéramos hecho enmienda poder transaccionar pero la verdad es que la enmienda de la señora garrido aunque nosotros estemos de acuerdo con el contenido

y creo que está haciendo un planteamiento diferente que no tiene nada que ver con la propuesta

por la que nosotros nos vamos a abstener a esa enmienda besterik ez eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

voy a ser bastante breve y lo voy a ser porque hoy no se está trayendo aquí el debate en relación

qué medidas tenemos que adoptar frente a enfermedades infecciosas frente a brotes de enfermedades infecciosas

de toda clase debate por cierto para que con total humildad yo voy a plantear aquí que me declaro científicamente no competente

en este parlamento lo que hoy se nos plantea por parte de eh bildu

en este parlamento para que en dos meses oigamos a algunos cuantos expertos y después tratar de negociar entre los grupos políticos

y en realidad esto se responde con un sí o con un no por eso no tenemos enmienda a esta iniciativa y nosotros vamos a votar no pero vamos a votar no precisamente porque somos consecuentes con ese reconocimiento que humildemente les he hecho

aunque sé que en ocasiones parece que tenemos que saber de todo

les he dicho que temas como estos son no tanto

además yo creo que es muy inocente pensar que en dos meses desde una comisión de estudio parlamentario por mucho que cada grupo político traiga dos o tres expertos se pueda aportar un plan con soluciones magistrales para hacer

epidemias y los brotes de enfermedades infecciosas simplemente se lo he dicho porque es más una cuestión no es tanto una cuestión política sino que es simplemente una cuestión científica y a eso se añade además la obviedad de que cada

cada posible pandemia tiene unos condicionantes y unas características muy particulares

ante otras enfermedades infecciosas ante otro tipo de pandemias podrían ser absolutamente inválidas absolutamente no necesarias por eso nos parece que también es demasiado inocente con esto yo no digo

que hacer nada claro que se tiene que hacer y usted señalaba que yo en ocasiones le he comentado pues la propia ley de salud pública

abordando la cuestión de llegar a la normalidad asistencial los diferentes ámbitos asistenciales

pero además es que nosotros en su momento cuando tuvimos que plantear el programa electoral

y recogimos la necesidad allá por julio del año pasado de crear un comité permanente para asuntos

y que era compartida por el partido nacionalista vasco se incorporó en ese acuerdo de gobierno y además es uno de esos comités científicos porque lo vuelvo a decir esta es una cuestión más de debate y de conclusiones científicas

ha planteado también y que venció el plazo hace escasos siete días

pero de verdad creemos que la gran mayoría de estas cuestiones no son de debate político

llevar a la arena de la política a la arena de las normas y a la arena de las instituciones aquellas cuestiones que desde la ciencia

para abordar esas cuestiones y con respecto a la enmienda del partido

de lo que usted plantea y algunas de ellas se están llevando a cabo la gran mayoría de ellas y de hecho bueno pues en algunos casos por ejemplo con el tema del covid persistente incluso hemos hablado en este

enmienda aprobada que es la postura mayoritaria de este parlamento pero como he dicho no somos enmendantes por lo tanto

el grupo proponente nada más y gracias eskerrik asko rico jauna

lo mismo le doy a la protección de animales que al covid hemeretzi gaur egungo

ahora ni pasado un año de conocer lo que el departamento de salud quiere hacer esta legislatura nos presenta una propuesta para crear un grupo de trabajo

una manera de hacer frente a brotes de enfermedades infecciosas emergentes y a pandemias y cito textual de todo tipo baina mesedez utzi sailari lan egiten en el departamento lleva escasos

al tiempo de luchar contra una pandemia que se desata de vez en cuando no pretenderá que le digamos

que ya vamos a debatir en este parlamento cómo hacer las cosas bien y ya si eso cuando acabemos se lo contamos

usted habla de trabajar en este parlamento sobre enfermedades emergentes y para empezar y aunque usted lo sabe

existe dependiente del departamento de salud un consejo asesor de enfermedades

pero eso es tan evidente que usted misma cita una expresión de un documento de ese consejo asesor para argumentar la propuesta que hoy debatimos en un borrador un borrador de diciembre de dos mil diecinueve se dice cito textual que usted lo pone tiene también la pretensión de impregnar al sistema sanitario de la comunidad autónoma de una cultura del buen hacer

de la transmisión de enfermedades infecciosas emergentes que permita a medio plazo establecer los criterios de sospecha de las mismas en función de presentaciones sindrómicas concretas en entornos epidemiológicos independientemente de que no existe una alerta

y resulta por pararme un momento en el asunto

al menos en su explicación del escrito presentado a la mesa que es un borrador como usted indica una frase de un borrador es una base sólida para crear un grupo de trabajo

usted nos ve a los miembros de la comisión los que usted conoce ayudándole a pensar sesudamente sobre las presentaciones sindrómicas concretas en entornos epidemiológicos

esto no quiere decir que si hay que ponerse yo me pongo

llevan toda la vida trabajando en el tema y quieren trabajar para avanzar e impregnar al sistema sanitario que no al parlamento con el nuevo conocimiento adquirido en esta pandemia que tantas sorpresas y tantos disgustos que nos viene dando

a partes iguales en todo el mundo incluso en nafarroa y en madrid donde ustedes también juegan a influir pero parece que allá no se les ha ocurrido sugerir esta novedosa idea

pero es que usted rebusca en borradores antiguos de comités asesores cuando no se ha parado a citar que el asunto que usted propone ya aparece concretado

y después otra vez plasmado en el programa del departamento de salud presentado a la comisión de salud en noviembre del dos mil veinte en ambos casos

permanente para asuntos epidemiológicos coordinado con el gobierno español y el organismo de coordinación que a tal efecto se constituya en la comisión europea compromiso que supone dar un paso adelante más allá del consejo asesor que usted ha citado y ese programa con ese y muchos más compromisos que no llevan ni un año desarrollándose

deberá ser el foro natural sin sacarse comisiones de la manga

espere a que llegue el proyecto y presente sus enmiendas para después en ponencia el lugar natural de una comisión de trabajo debatir

además para el debate de esa ley puede traer a todas y todos los expertos que usted quiera mientras que al grupo de trabajo

el artículo del reglamento en el que usted se basa para crear esta comisión solo permite traer un número no superior a la mitad de los miembros de la comisión en este caso serían como mucho ocho expertos por cierto y

enmiendas que usted presentó a la ley antipandemia covid diecinueve

era un catálogo de enmiendas que proponían una nueva ley anti todas las pandemias me imagino cuál será su ocurrencia para trabajar con las enfermedades

de prestigio sin decirnos el método de selección y cuando ya esté

mande mande sobre todo y decida sobre aforos cierres horarios y cuantas cosas quiera decidir para después mandárselo al consejo de gobierno y que el lehendakari sin posibilidad de debatir aquella propuesta

el modelo puede parecerle a usted estupendo si no no lo hubiera plasmado en sus enmiendas pero a mí y a nuestro grupo nos parece un espantajo

casi mejor que no empiece sus trabajos mientras tanto el gobierno y nuestro grupo parlamentario trabajamos para además de solucionar las cosas

legislatura se comprometió el departamento de salud por eso esperamos a la ley de salud pública para debatir sus contenidos en la ponencia correspondiente

las diferentes cuestiones que van surgiendo y que no dejan de ser concreción de los compromisos del gobierno al principio de esta legislatura ahí tiene la enmienda

que cree ese comité permanente de asuntos epidemiológicos previsto en el programa de gobierno para diseñar

para qué hacer un grupo de trabajo cuando todavía le toca al gobierno elaborar sus estrategias para qué un grupo de trabajo cuando en unos meses llegará la ley de salud pública y se constituirá la correspondiente ponencia

un comité permanente de asuntos epidemiológicos como ve

somos más de dejar que el gobierno nos convenza a base de ir desarrollando lo que al principio de la legislatura nos dijo que iba a desarrollar eman denbora

mahaigainean este grupo cuando analizó la propuesta

o presentar alguna enmienda elegimos la segunda opción por considerar

plantear cuestiones específicas en las que entendemos que hay que profundizar en estos momentos como pueden ser reforzar las unidades de vigilancia epidemiológica

revisar la estrategia de atención primaria profundizar

persistentes para dar una atención de calidad a estos enfermos contar con un órgano que creemos eso sí que no se ha contado de forma suficiente con él como es el consejo asesor de enfermedades infecciosas emergentes que además tiene un informe por lo tanto creemos que en cierta medida a poder incluso

llevar a duplicar ese trabajo cuando ya hay un informe que se puede completar que se puede actualizar por parte de unos expertos que iniciar aquí una comisión con comparecencias con un plazo además de dos meses que entendemos que sus resultados

existen y que están trabajando en esta cuestión desde hace tiempo

no voy a poner jamás en duda que usted lo que trae aquí lo trae con convencimiento y porque cree que es lo mejor que puede traer pero lo que no

es que usted ponga en duda que lo que los demás pensamos lo pensemos de verdad y que además lo que nosotros venimos aquí a proponer es simplemente porque como acaba de decir no queremos trabajar lo dicho y me parece tan terrible

cuál es la vocación que usted tuvo para venir a este parlamento yo le puedo decir la mía y la de mis compañeros y compañeras que es la de trabajar y mucho no hemos dejado de trabajar

durante toda la pandemia en los momentos incluso en los que este parlamento no estaba reunido se acuerda en el confinamiento usted y yo coincidimos en algún órgano se acuerda

yo creo que es algo que nos queda a los demás grupos y tener nuestras propias posiciones

y no se sienta ofendida cuando le décimos que esa no es la vía mire yo le voy a poner el ejemplo más claro de por qué esta no es la vía

que en una comisión parlamentaria en dos meses pasando por aquí tres o cuatro expertos podemos acordar de verdad un plan

y todo tipo de epidemias es que yo creo que ya solamente el planteamiento me lo va a permitir

es ridículo es ridículo porque no lo ha conseguido la ciencia no lo vamos a conseguir nosotros es que si usted y yo acordamos que por ponernos un bolígrafo en la mano

esa es una solución para algo por mucho que lo llevemos a un texto o lo llevemos a un plan parlamentario eso no va a ser la solución de nada en la ciencia

no es un debate político es un debate científico y en estos momentos en los que una pandemia nos ha demostrado que la ciencia y la política tienen que ir de la mano yo no entiendo por qué usted lamenta tanto

no porque queremos que sea un comité científico quien lo decida

no lo entiendo con esta intervención lo único que le quiero pedir es respeto para el trabajo parlamentario que desarrollamos el resto de los grupos parlamentarios

muchísimo al menos tanto como ustedes eskerrik asko

rápido aunque no era una proposición suya señora garrido

ha hecho una cosa que hace habitualmente no tiene nada que ver con la propuesta hecha ha lanzado un

nada tenía que ver con la propuesta de la señora ubera y se ha encontrado con que esta vez nadie había presentado una enmienda que usted suele aprovechar normalmente para que otro grupo presente una enmienda mi amigo hernández ha caído varias veces en ello se ve que va aprendiendo y ya no presenta enmiendas

y terminar por apoyar una enmienda que se ha transaccionado con bildu pero bueno esta vez no le ha salido y se ha quedado en manzanas traigo

pues será que no queremos trabajar pero el problema es que usted confunde

la cantidad de proposiciones no de ley de mociones de cosas que lanza

ya no lo sé mire

no querer hacer política qué estamos haciendo aquí y cuando le décimos que esa comisión no tiene sentido estamos haciendo también política

o se decida que es lo que yo le he dicho que yo no me siento capaz de hablar de presentaciones sindrómicas

pero yo no quiero hacer política hablando de presentaciones sindrómicas

debatiendo leyes y dejando al gobierno que haga política haciendo la política de lo que se comprometió no hace ni un año

sindrómica para decirle cómo lo tiene que hacer mire esto no es el modelo y claro y luego además y ahí también ha entrado el señor hernández usted dice que quiere hacer

trabajar en las presentaciones sindrómicas y en no sé qué de epidemiológico

que hay que hacer una reflexión profunda el señor hernández ha dicho

sobre si hay que hacer una reflexión profunda sobre lo que hemos hecho y luego habla usted de que es una actuación partidista mire es trabajarlo con técnicos

vale al decir eso quiere decir usted que este grupo parlamentario

usted cree que trabajamos desde esa perspectiva o es más que nada que usted ha visto sigue viendo todo el virus desde su lupa anti pnv será eso

el gobierno ha venido haciendo todo el tiempo un trabajo basado en las documentaciones de técnicos y expertos y seguimos hablando de técnicos y expertos y luego ha hablado usted de algo eso sí

porque ya le he dicho que usted confunde estar ocupado con trabajar pero cuando habla de ejercicio democrático

eso sí me duele más porque eso como no me hace trabajar pero sí me hace pensar mire no es todo el trabajo que está haciendo el gobierno no es democrático

no es un gobierno que viene de una democracia de unas elecciones democráticas y que además le hemos apoyado en este parlamento que es democrático que no haya una comisión que estudie lo sindrómico eso es no hacer un ejercicio democrático a ver si usted pone límites a dónde están los ejercicios democráticos muchas gracias